kalean izan zirelako asamblea nacional catalana deituriko

es que todavía hay quien propone que los conflictos y diferencias políticas en democracia se resuelvan a las bravas

es que tenemos oportunidad de decir que en euskadi defendemos el diálogo y el pacto y que defendemos que nuestra capacidad de llegar a acuerdos sea sometida al criterio de los ciudadanos en las urnas pero con garantías de que sea útil y no genere frustraciones innecesarias eso es lo que debatimos hoy y lo que hemos debatido en muchas otras ocasiones porque esto no es nuevo

lo que ya habíamos dicho antes los socialistas es que hay que sacar la política

porque ni el procesamiento de cargos públicos ni en su caso la decisión judicial que se pueda tomar sea cual sea van a resolver el problema en el que viven sumidos los catalanes desde hace ya demasiado tiempo no lo va a arreglar un juicio en el que se van a contraponer las movilizaciones ciudadanas por encima de los criterios de derecho que utilicen los jueces

ni una condena nada de eso tiene que ver con el hecho de que cataluña requiere una revisión

en el proyecto común de españa porque hay un procedimiento para hacerlo sin dividir a los catalanes aunque eso no calme ni las aspiraciones máximas de una parte de esa comunidad quienes niegan la mayor y quienes niegan cualquier cosa que no sea su tesis se equivocan en uno y en otro lado

cada día se desvela algo que intenta condicionar el problema catalán en un sentido o en el otro cada día una fecha nueva para la consulta

y lo importante los ciudadanos catalanes esos en un rincón

cede escaños para unos presupuestos llenos de recortes y de tesis conservadoras porque incluso para los anticapitalistas la nación se superpone a la revolución un representante de un partido en el gobierno desvelando supuestas prácticas de tráfico de datos personales de los ciudadanos

que todos esperamos que no sea cierto un presidente del gobierno catalán fracasando en cada intento de aglutinar apoyos a su causa en el exterior y un presidente del gobierno de españa que ha permanecido de brazos cruzados hasta el momento

y han distraído a los catalanes de las políticas de bienestar y de la lucha contra el paro que son las que necesitan porque le quiero recordar una cosa respecto a aquella manifestación que usted hablaba de la diada de dos mil doce en aquella manifestación hubo muchísima gente muchísima gente que reclamaba la independencia

de los dos hubo en aquella manifestación y eso se sigue manteniendo y al final lo que hacen los dos es subirse en sus responsabilidades de buscar soluciones a estas cuestiones

entre las distintas formas de sentirse catalán porque existen distintas formas de sentirse catalán como existen aquí distintas formas de sentirse vasco ni la independencia

que ha sido el detonante último de los problemas de financiación y que ha hecho reventar un problema político y resuelto en cataluña esas consecuencias se arreglan con propuestas en positivo para regenerar un país

recuperar derechos sociales perdidos por ese mismo gobierno que ahora defiende la independencia y buscar el acuerdo para que los catalanes sigan sintiéndose cómodos en el proyecto común de españa y de europa y somos conscientes no podemos dejar de hacerlo de que los nacionalistas siempre van a estar relativamente incómodos

sus fines últimos son otros pero son fines últimos de una parte muy respetable de la sociedad

por el todo cataluña y desde luego quienes gobiernan no se pueden saltar las normas se pueden cambiar pero no saltar

pero no nos vamos a saltar las normas y no es una apelación a la legalidad es una apelación a la política a la política pura a la política de verdad a la política útil a ejercer las responsabilidades que nos otorgan los ciudadanos cuando nos votan

y que tan ampliamente fueron respaldadas por los propios catalanes en todo el proceso autonómico y apostar por las política pura y asumir nuestra responsabilidad es huir del blanco

en la que está instalado el discurso político en cataluña tsipras también consultó

y ganó y al día siguiente siguieron las colas en los bancos y dos años después los griegos son más pobres que entonces

ganó pero nadie duda de que la cuestión escocesa

pendiente de resolverse y que en breve probablemente tiene usted razón tendrá nuevos capítulos

y aun estamos pendientes de saber las consecuencias que eso va a tener para todos los ingleses y el resto de europeos y esa decisión se tomó probablemente con demasiada alegría pero desde luego lo que no era era la solución para los problemas de los británicos y ahora lo están diciendo los propios británicos

a costa de prohibir la entrada a mejicanos a musulmanes ganó es verdad pero no creemos que eso haya sido ni la solución para los problemas de los

ni tampoco para los derechos humanos las decisiones políticas complejas y esta lo es no se resuelven con respuesta sencillas eso es un error político de bulto

dos posibles mensajes una voluntarista tan llena de ánimo nacional

que culmine en una consulta a los ciudadanos vinculante para a ver si avalan o no el esfuerzo de los responsables políticos porque nuestra obligación es intentar llegar a acuerdos y las consultas tienen que servir para refrendar acuerdos previos no para sancionar divisiones anteriores nosotros ofrecemos

porque aquí ya nos curamos de algunas tentaciones peligrosas y algo sabemos de esto de generar frustraciones y abrir fosos de desconfianza que luego cuesta mucho taponar

que los vascos queremos un proyecto compartido con cataluña y con el resto de los pueblos de españa que reconozcan nuestra pluralidad nosotros queremos para cataluña lo mismo que queremos para euskadi y en euskadi más allá de debates emocionales y este lo es y mucho hay un gobierno que se ha comprometido a respetar el ordenamiento jurídico vigente porque eso es lo que da seguridad a las decisiones que se adoptan y la seguridad es lo que va a ser útil de verdad a los ciudadanos por eso queremos invitar al resto de grupos a que respalden nuestra enmienda

al conjunto de los catalanes que la iniciativa propuesta originalmente que será aplaudida por muchos catalanes y probablemente despreciada por otros tantos

señoras y señores consejeros egun on guztioi

además de ser un debate que ya lo hemos sustanciado desde varios enfoques en esta cámara es verdad que

siempre tengo muchos reparos a la hora de pronunciarme

sobre encausamientos porque uno tiene cierta tendencia a respetar con especial intensidad la separación de poderes desde el máximo respeto

incluso sobre sentencias judiciales cuando gustan y cuando no cuando estas se producen pero insisto también en los procesos orales cuando se abre juicio oral sobre alguna circunstancia pero

este respeto entrando en el fondo de la cuestión al final el fondo de la cuestión de lo que usted plantea porque el doble enfoque

insito esta cámara poco tiene que pronunciarse sobre un procedimiento oral abierto sobre la presunción de un delito cometido en este caso

al que se acusa por cierto en este juicio oral de nada más y nada menos que desobediencia y prevaricación

en la que pide que este parlamento juzgue desde ya la imposibilidad de ser juzgado un dirigente político por la comisión de delitos

porque además luego también entraríamos en una cadena peligrosa en virtud de la cual el representante del pueblo

en la posibilidad o la imposibilidad de juzgar penalmente a aquellos que se dedican a la política y esto

especialmente delicado pero sobre el aspecto político sí hay algo que decir y sí cabe

que ha sufrido especialmente la discrepancia política somos una tierra que ha sufrido especialmente

inoperancia o por la actitud en ocasiones de la propia política de lo que ha proyectado la política a la ciudadanía somos una tierra que ha sufrido especialmente el terrorismo que ha sufrido la violencia en muchas manifestaciones y con muchas caras que ha sufrido guerra de símbolos guerra de banderas que ha sufrido

hemos sufrido cómo familias se han enfrentado por la política hemos sufrido cómo grupos de amigos se dejaban de hablar por culpa de la política

yo creo que afortunadamente pasada tenemos que consolidar ese salto

en aquella época uno iba a barcelona iba a cataluña

de sentimientos de pertenencia veía cómo en cataluña se vivían con normalidad

contrapuestos pero en cualquier caso existía una convivencia normalizada en cataluña y algo está pasando algo ha pasado y algunos responsables políticos hay

hoy las tornas parezca que estén cambiando algún responsable político hay en cataluña para que hoy en euskadi se abra un espacio político social y de convivencia esperanzador y en cataluña se involucione

a lo peor de lo que nos sucede en euskadi porque hoy la convivencia en cataluña entre catalanes no me refiero de catalanes con el resto de españoles de cataluña con el resto de españa la convivencia entre catalanes es peor de la que había hace diez años o quince años

hoy la política en cataluña es objetivamente peor de la que había hace diez o quince años no solo decisiones políticas nefastas fundamentalmente la mayor parte de ellas

han conseguido que por ejemplo un partido político con una amplia responsabilidades en el pasado de gobierno y de gestión haya desaparecido o que un gobierno

que a usted señor urizar le dejan a la altura de una ursulina en cuanto a radicalidad no solo que ese gobierno

no solo que ese gobierno tenga unos presupuestos en manos de ese partido radical que senadores que políticos catalanes hagan ostentación de incumplimiento de la ley de que tienen los datos de los ciudadanos de que

no solo de que los casos de corrupción que han aflorado también en el establishment catalán

no solo porque tengan un gobierno que no se dedica a legislar ni a gobernar ni a gestionar

como de las actas de las reuniones de gobierno se desprende sino que el objetivo único único

todo esto tiene responsables seguro que son muchos pero quienes han gobernado y quienes han metido a cataluña y a la política catalana y con ella a la sociedad catalana en esta senda

es artur mas entre otros pero su responsabilidad es inexcusable y que se venga a esta cámara a pedir el pronunciamiento de estos grupos parlamentarios

oral en este momento abierto que proyecta la sombra de sospecha porque artur mas es inocente hasta que se demuestre lo contrario jurídicamente es inocente hasta que se demuestre lo contrario

y que artur mas tenga la capacidad de hacer lo que le dé la gana y cualquier otro dirigente político tenga posibilidad de hacer lo que le dé la gana

sino que además lo que se plantea en esta cámara es un aplauso político a una realidad social y política de la que tenemos que huir en esta sociedad y en cualquier otra que se presente moderna como de la peste yo no quiero nosotros no queremos que euskadi se parezca

no queremos no queremos que la política vasca proyecte sobre la sociedad vasca lo mismo que la política catalana y sus políticos irresponsables han proyectado sobre la sociedad catalana y sobre esto es lo que hablábamos hace unas semanas y decíamos que era una referencia o la semana pasada creo recordar

sobre lo que nosotros creemos que tenemos que tomar una nota señor urizar yo entiendo que ustedes tienen las referencias políticas

un objetivo político y entiendo que además esas referencias políticas y ese objetivo político para su consecución les valga casi cualquier cosa y yo entiendo que a ustedes esto del cumplimiento de la ley

eso lo entiendo como también entendemos que su modelo de desarrollo social y político sea mucho más parecido

pero sino dejamos bien claro que artur mas

por razones objetivas como las que he descrito de lo que esta sucediendo en cataluña desde luego correremos el riesgo

de caer en los mismos errores en los que ha caído la política catalana y esto no puede ser la política no se pueda convertir en un problema los políticos no pueden generar problemas

son problemas políticos y sociales y esto esto proyecta sobre artur mas una condena política de primer orden es culpable

en cataluña jurídicamente veremos qué es lo que dice el tsj muchas gracias eskerrik asko sémper jauna

estamos totalmente en contra de que ningún cargo electo o institucional sea encausado procesado

para que la voluntad de la ciudadanía se manifieste de manera democrática y esto sirve para el señor artur mas para carme forcadell

representante de la ciudadanía en segundo lugar consideramos que la forma en la que el gobierno del partido popular con el apoyo indisimulado del partido socialista está afrontando las demandas de una mayoría social en cataluña para poder revisar su estatus territorial y poder decidir es absolutamente desastrosa ineficaz frentista y destructiva pero más aún como se ha comprobado ha sido en muchos momentos antidemocrática

al respecto ya es de sobra conocida lo defendemos en cataluña lo defendemos en euskadi y lo defendemos en todo el estado

es un principio democrático sin embargo también creemos que artur mas

es una persona a la que concurren muchas circunstancias citaré dos muy evidentes la primera

sobre corrupción en el govern de la generalitat y en su propio partido la segunda

ha sido la de aplicar algunos de los mayores recortes sociales a los que hemos asistido en este sentido nuestro voto a la proposición de euskal herria bildu

creo que queda medianamente clara nuestra posición ya quedó clara en esta misma cámara hace unos meses cuando hicimos una rueda de prensa conjunta

cuando fue enjuiciada no tenemos ninguna pega al respecto pero en esta abstención también pesa

a cómo entiende el derecho a decidir circunscrito a lo territorial en una clave que se intuye unilateral y que nosotros respetamos y creemos que es legítima

del texto presentado pero dejamos muy clara nuestra defensa de los representantes políticos catalanes encausados por impulsar una consulta nuestro apoyo al derecho a decidir y nuestra visión extraordinariamente crítica frente al proceder del gobierno de mariano rajoy en esta cuestión

opción de poder contrastar nuestros diferentes puntos de vista sobre el derecho a decidir en la ponencia de autogobierno y confiamos en que podamos llegar a acuerdos pero hoy no toca consideramos

cataluña tiene la gran virtud de ser un valor permanente cataluña es porque sus hijos sienten la tierra hablan su idioma son catalanes

de aquí que cuando los acontecimientos parecen haber desorganizado las ilusiones políticas hoy como ayer la catalanidad con su valor de permanencia

hay quienes presentan a los catalanes como políticamente turbulentos atribuyendo este hecho a la influencia de un individualismo exacerbado que ha dado entre otros resultados el nacimiento de un movimiento libertario de pujanza deducen de ahí que cataluña no es factor de orden ni capaz de dirigir un proceso constructivo

no solo por afecto que los catalanes conocen bien ni por consideraciones de afinidad política que también son importantes sino por mi admiración por esa

y que me lleva a creer en cataluña como factor de orden y de progreso más aún el genio catalán ha modelado el alma

que su defensa constituye las páginas más brillantes de la historia de cataluña

han quedado nuevamente consagrados en nuestros días a través de la sangre del dolor y del sacrificio cataluña es y será así me lo decía el once de septiembre del treinta y tres yo había sido comisionado dice por mis compatriotas para acudir en su representación a la ceremonia conmemorativa de aquella fecha gloriosa la celebración de la diada

cuánto me había emocionado el entusiasmo y el aplauso espontaneo con que el pueblo le había recibido a su llegada al pie del monumento a casanova y cuánto valor tenían los sentimientos enraizados definitivamente el alma del pueblo cataluña es y será

con aquella profunda convicción que reflejaban sus palabras

hombre ilustre me decía hubiese sido lo mismo que yo no hubiera existido porque cataluña ya hubiera encontrado los hombres adecuados para este momento

en el futuro porque cataluña es y será y en efecto

no porque yo lo desee solamente sino porque cataluña como valor permanente no encontrará jamás cerrados definitivamente

pronto se darán las circunstancias favorables en las que esta libertad será de nuevo organizada para bien de cataluña y de los demás pueblos peninsulares

jamás recibió la tierra de cataluña semilla más ubérrima el fondo permanente que corre a través de su historial recibió con ello consagración definitiva

que este voto surja de un vasco nada tiene de extraño

el destino ha marcado un rumbo a nuestros pueblos como portavoces de hondos anhelos contra toda clase de opresión y tiranía que sepamos ser dignos de ella recordando

he querido remover estos recuerdos que son siempre gratos porque demuestran que la fe

es capaz por sí sola de mantener en pie el espíritu de los pueblos y si la voluntad es puesta en acción a su servicio entonces se ha encontrado definitivamente el camino de la libertad

vicepresidente del tribunal constitucional y presidente del consejo de estado

yo traigo una referencia porque él también intervino en esa dirección aquí pero ha tenido unas expresiones

con respecto al proceso catalán y dice textualmente si una minoría territorializada desea la independencia

impide oponer a esa voluntad obstáculos formales que puedan ser eliminados

si la constitución lo impide habrá que reformarla dice pero antes de llegar a ese extremo añade

la existencia y la solidez de esa supuesta voluntad y no hay otro camino que el del referéndum esto lo dice

fuera presidente del consejo de estado durante tantos años y vicepresidente del tribunal constitucional apelando al principio democrático yo me pregunto existen obstáculos formales

evidentemente sí se puede conocer

o el apoyo a la independencia es sólido se puede conocer cómo a través de la consulta a través del referéndum luego la vía es consultar es preguntar

a la consulta no le preocupa tanto la pregunta como la respuesta y un gobernante que en esa aplicación desde esa prohibición esconde esa cobardía política tiene que afrontar también su propia responsabilidad

porque puede tener no sé qué respuestas se ha hablado de la proporcionalidad de esas respuestas según sean los actos jurídicos o políticos que vaya a adoptar el gobierno de la generalitat o en su caso el parlamento

salida es consultar es preguntar y como dice rubio llorente no se pueden oponer a esa voluntad obstáculos formales y ya es hora ya es hora de ir

lo que se ve lo que existe que no hace falta inventarse nada hay hechos nacionales no reconocidos como tales que existen en la península en el estado español y al gobierno español o a los poderes del estado les toca

los modelos o los ejemplos de cameron de trump verdad las preguntas simples no deben de generar soluciones

quizás no y no preguntar genera soluciones está haciendo apología de no preguntar

tampoco encuentra las soluciones que necesita dentro de casa por lo tanto yo creo que tampoco

ondo goaz trasladaba que el cumplimiento de ley debe de ser

nosotros creemos que hay que trabajar bajo unas normas pero el límite

el límite lo tiene que decidir el pueblo y el pueblo catalán tiene derecho a marcar cuáles son los límites legales y no lo tiene entiendo yo que el gobierno español para impedírselo por lo tanto no puede ser

no puede utilizarse para imponer mediante amenazas los criterios del modelo español rechazamos claramente

del gobierno español trasladando que precintará los colegios electorales si se da que esa consulta o que irán más allá suspendiendo la autonomía la rechazamos de pleno la sociedad escocesa y la catalana

han ganado porque han decidido que su futuro esté en sus manos nos decían

y eso ya es una realidad euskal herria también va a seguir recorriendo ese camino no tengan ninguna duda una forta

les que per una catalunya independent

gran manifestación de la diada del dos mil doce masiva yo creo que aquello provocó dos cosas coincidimos en que hay había gente que estaba en la manifestación por motivos distintos

y otros porque estaban muy cabreados por las políticas de recortes de la generalitat por qué empezó a derivar desde allí

y entonces decidió que el mejor camuflaje para que no se hablase de los recortes de la generalitat era envolverse en la estelada y tapar cualquier tipo de crítica social que la había

muy tapada y muy anulada en cataluña porque se habla solo de lo que los nacionalistas quieren que se hable

de verdad a los ciudadanos yo no soy partidario de los juicios y los procesamientos como el que se ha puesto en marcha me parece que es un error político

ante estas situaciones de forma racional aquí lo vivimos aquí fue encausado el lehendakari ibarretxe

y la respuesta que se dio desde uno y otro lado fue radicalmente distinta

respondimos con preocupación pero también con respeto y con tranquilidad

y critico airadamente la decisión judicial yo creo que las cosas hay que ponerles siempre cierta medida después aquí se pone siempre una imagen que yo entiendo que en fin los que se definen como nacionalistas les entusiasma es hablar de los pueblos como un ente en marcha

para nada ese criterio yo creo más en los ciudadanos libres depositarios de derechos civiles y políticos que se expresan como quieren

que tienen que hacer esa es la euskadi y la cataluña que yo defiendo

de derechos no la de entes colectivos que anulan cualquier tipo de diferencia

porque creemos en la ciudadanía y porque creemos en un concepto básico nadie puede construir una nación ni la catalana ni la vasca partiendo de un criterio

en el mundo que se construya sin un pacto previo si no existe ese pacto si se niega siquiera la posibilidad de intentar el pacto la nación por mucho que ustedes se empeñen

será una ficción será una entelequia será un recurso emocional

hagan ustedes el esfuerzo de racionalidad y transmítanlo a sus compañeros catalanes de que no hay cataluña que se construya como nación

hagan por lo menos el intento nosotros estoy seguro que lo vamos a intentar hasta el último momento eskerrik asko pastor jauna euskal talde popularra sémper jauna zurea da hitza

yo lamento mucho le confieso que me ha sorprendido incluso que el partido nacionalista vasco

se lo digo me sorprende mucho que el partido nacionalista vasco vaya a votar a favor de la proposición no de ley que presenta bildu

me sorprende profundamente me sorprende profundamente porque yo creo o

la defensa de determinadas posiciones políticas pero desde el respeto escrupuloso a la ley

desde el respeto a las normas de las que nos hemos dotado para convivir desde el respeto a las normas que nos hemos dotado para convivir y desde su defensa incluso desde la voluntad de cambio o desde la voluntad de reforma o transformación pero bueno no sé yo el señor egibar nos ha citado al lehendakari agirre

pero a mí volviendo al dos mil diecisiete señor egibar y al futuro apasionante que nos queda por delante

nada bueno que merezca nuestro aplauso y nada bueno que merezca nuestra copia

tenemos que huir de lo que ha sucedido en cataluña

de recuperación de la interlocución política de la convivencia de la estabilidad del entendimiento entre vascos

en cataluña exactamente lo contrario y si ustedes comparten esto que después de escucharle creo que no podremos llegar a entendimientos y podremos avanzar con estabilidad y serenidad claro el problema

es cuando solo citas partes de lo que te gusta de lo que dicen claro

pues como todo en esta vida oiga tiene posiciones políticas o manifestaciones algunas que te gustan y otras que no lo que no vale es decir me interesa lo que dice el presidente del consejo de estado de turno y lo cojo cuando me gusta pero cuando no digo que el consejo de estado es un órgano que no funciona y que no tiene ningún interés lo mismo que no vale decir aplaudir determinadas sentencias judiciales cuando

los tribunales están manipulados que son políticos cuando se posicionan

es la ley de la selva de la que tenemos que huir porque el señor

retóricamente o afirmaba mejor dicho los límites no son las normas cómo que no cómo no van a ser las normas los límites

los marcos de los que nos hemos dotado para que personas que pensamos de manera diferente podamos en la plaza pública y también en este parlamento ponernos o intentar ponernos de acuerdo

señorías y estoy de acuerdo con usted señor pastor que en junio del año dos mil once

y un buen número de diputados catalanes tuvieran que entrar en el parlament de cataluña con motivo del debate de presupuestos

y tuvieron que entrar porque había una parte de la ciudadanía catalana que se manifestó a nuestro juicio de una manera profundamente equivocada en las formas pero que se manifestó contra precisamente la política que estaba desarrollando el gobierno de cataluña en materia económica y social

con rotundidad y con determinación contra esa política social y económica que estaba desarrollando el gobierno de cataluña oiga desde junio del año dos mil once

de política social nunca más no de esa manera

y esto hay que reconocerlo con habilidad la casta dirigente catalana consiguió desviar la atención sobre la nefasta gestión que se estaba desarrollando en cataluña y poner el acento en el debate identitario

de extender el debate de forzar la cuerda y llegar al punto en el que estamos ahora un punto de no retorno para los propios políticos catalanes porque a pesar de las apelaciones y de los llamamientos al entendimiento y al diálogo

en el que tienen difícil decir que esa épica que han abanderado a pesar de los ofrecimientos de diálogo y de entendimiento para resolver los problemas que son los que de verdad tienen los ciudadanos catalanes ya no tienen capacidad de dar marcha atrás y este es el verdadero problema al que nos enfrentamos y da igual da igual

van a un callejón sin salida a darse contra el muro

ni este ni los que vengan no lo tienen quienes defienden la ley y la convivencia

porque lo contrario sería estar al albur de las decisiones puntuales del gobernante de turno y eso sí que sería la ley de la selva

es mentira es mentira no es cierto que las últimas elecciones catalanes el resultado

de manifiesta apoyo a la independencia no es cierto repase usted las cifras pero da igual

si es que les da igual me consta al señor mas le da igual es verdad si no le importa a los independentistas catalanes les da igual si lo sabemos pero afortunadamente en un estado democrático y social de derecho como es el nuestro como españa por encima de la voluntad de artur mas por encima de la suya

está la voluntad democrática expresada en las leyes de las que nos hemos dotado que se pueden cambiar pero eso si no gustan hay que cambiarlas

yo iba hacer la intervención tranquila pero la verdad que con el último turno

un debate sobre el derecho a decidir un debate sobre el proceso y sobre todo he oído

de pacto de convivencia ha dicho usted hace un momento señor sémper que el gobierno de españa no tiene un problema con esto

quien debe ofrecer un marco bilateral un marco pactado y un marco legal

permitir que las que obviamente son naciones dentro de un estado puedan decidir de qué manera quieren o no encajar dentro de ese estado porque obviamente existen una serie de voluntades nacionales y que tienen como base un principio democrático para poder decidir de manera voluntaria su adhesión o no al estado y el modelo que quieren si de una manera

se judicializan los procesos políticos se recurren

se agravia en base a los métodos más antidemocráticos cualquier decisión que pueda tomar un parlamento autonómico pues

cómo no se van a fomentar una serie de problemas de convivencia y división social que por mucho que usted insista en que

parte de responsabilidad tiene desde luego la espalda que le da el gobierno español a cualquier tipo de proceso democrático de derecho a decidir y de avance

pues desde luego es uno de los grandes provocadores de este problema

es el agravio democrático que hace de manera sistemática el gobierno español a cualquier

al margen de eso nosotros ya está claro que defendemos un estado plurinacional que defendemos un estado plurilingüe y que defendemos el derecho a decidir

nosotros proponemos un proyecto común proponemos

pero lo que no se puede es obligar a un pueblo a pertenecer a un modelo

con preguntar cosa que ya ha dicho pello sí que el señor pastor parecía que tenía algún problema con las preguntas

cuando son claras como por ejemplo sucede con el modelo canadiense lo único que llevan es a un ejercicio democrático de calidad de avance y de una sociedad avanzada yo creo que no debería de haber ningún miedo y ningún problema a hacer este tipo de ejercicios democráticos de calidad y desde luego que sean vinculantes que no solo sea el ejercicio de

luego eso tenga un efecto político pero cuando se hacen las cosas de manera establecida de manera pactada de manera bilateral y de manera clara

ningún tipo de problema pero como ya he comentado antes creo que

en la ponencia de autogobierno que ese es el espacio para debatir y para desarrollar también el modelo que queremos aquí

esta y otras muchas frases de francisco rubio llorente se lo voy a volver a leer porque yo creo que aplicado

creo que merece ser cuando menos además de conocida ser respetada si una minoría territorializada desea la independencia

el principio democrático que es la combinación de legalidad y legitimidad impide oponer a esa voluntad

y ustedes están en los obstáculos formales si la constitución lo impide habrá que reformarla

hay que averiguar la existencia y la solidez de esa supuesta voluntad y no hay otro camino que el del referéndum porque ustedes evidentemente tienen senda institucional

ningún problema es evidente que lejos de haber apostado por una línea de trabajo de profundización democrática

en la senda institucional todavía tienen resortes además de lo que puede ser la disolución

que por decencia democrática tenía que haber sido derogada hace muchos años las formaciones políticas que pactaron

que es el equivalente a la inscripción que tenían los reyes en sus cañones

la última razón de los reyes es el uso de la fuerza eso está consagrado en la constitución española luego tiene usted

pruebe porque se dará cuenta que en cataluña después de esta década transcurrida el auténtico motor

una humillación colectiva lejos de caminar por la vía del respeto del diálogo y del acuerdo se ha ido por la vía de la humillación

porque eso que dicen que van a hacer es ilegal y que no lo va a permitir nik uste dut puntu honetara iritsita nik behintzat

al igual que euskadi es y será cataluña y euskadi

son naciones son sujetos políticos y jurídicos que quieren definir y decidir su futuro libre y democráticamente y cuando décimos

serán los vascos y vascas catalanes y catalanas quienes definan y decidan el futuro de forma democrática y el principio democrático que obliga a la bilateralidad procurará el escenario de negociación de los extremos de lo que se haya dirimido en esa consulta

y puede ser que haya que dirimir los encajes y los ajustes que requieran una independencia

que no se pueden oponer obstáculos formales

que si son obstáculos formales hay que dar cauce y pie para que esa voluntad sea contrastada y si es mayoritaria evidentemente no solamente dar cauce

en el ordenamiento jurídico es lo que está pidiendo cataluña hori da azkenean bai artur mas eta bere

herriari galdetzea el que niega la consulta no quiere conocer la verdad y un político

debe conocer la verdad la verdad de cataluña la verdad de euskadi y la verdad en su caso también de galicia eskerrik asko egibar jauna

es tolerable lo décimos por varias razones por los efectos que tiene en la salud como un mayor riesgo de padecer enfermedades

mayores lo décimos también por los efectos que tiene para los consumidores más vulnerables porque no solo ya es sangrante que no tengan dinero para pagar las facturas sino que en muchos casos

con el efecto perverso que tiene para estas personas lo décimos también por los efectos que tiene sobre la calidad de vida

que estas situaciones lo que haga es destinar más dinero al gasto energético y menos a cualquier otro

etcétera y también lo décimos por los efectos que tiene sobre el medio ambiente porque los hogares con ineficiencia térmica

y medioambiental se calcula que el treinta y tres por ciento de las emisiones de los hogares

térmica por eso es tan importante y así también lo reconocía el propio consejero arriola esta misma semana en la comparecencia de la comisión de vivienda es necesario y urgente una rehabilitación profunda con eficiencia

nuestras viviendas si esta situación

de necesidades sociales del gobierno vasco señala un incremento significativo en los últimos años de los efectos a los que me he referido por ejemplo en el año dos mil catorce las personas que tenían problemas para mantener una temperatura adecuada en su hogar ascendían a cerca de doscientos treinta y cinco mil cuando en dos mil ocho

la ciudadanía vasca que es incapaz de calentar su hogar

que es la temperatura la que señalan los expertos que es la adecuada se ha incrementado

datos del propio gobierno vasco desde el inicio de la crisis por otro lado y no menos es cierto que la electricidad en el estado español es una de las más caras de toda

en españa en el estado español sigue subiendo por encima de la media europea

de los precios y de la subida de precios desde la que era tan beneficiosa liberalización del mercado eléctrico pero solo observando los datos del mes pasado de enero de dos mil diecisiete vemos como doce millónes de consumidoras las que están sujetas a la tarifa regulada pagaran de media sesenta y seis euros frente a los cincuenta y dos que habrían pagado o que pagaron en enero

es decir catorce euros más un veintiséis por ciento más en solo un año y estos incrementos son muy por encima de los que ha habido en europa porque podemos aceptar

pero no menos cierto es que el sistema eléctrico y tarifario que hay en el estado español y de producción de la energía favorece esas subidas por encima de la media si se cuenta desde el año dos mil seis hasta los últimos incrementos en las facturas de los pequeños consumidores estamos hablando

muy por encima del cien por ciento creo

se hace a todas luces o demuestra a todas luces que esa cifra muestra el escándalo y el negocio indecente

las eléctricas eléctricas que por otra parte son opacas que no ofrecen datos para cuantificar el número de clientes que no pagan pero cierto es que los ayuntamientos los servicios sociales las organizaciones sociales cada vez afrontan más casos

pagarlas y esto se hace mientras

multimillónarios y estamos de acuerdo y nos felicitamos por ello que en esta propuesta no de ley en el acuerdo que hemos alcanzado entre las cuatro fuerzas políticas que mientras no se cambie la legislación estatal sean las instituciones públicas vascas las que afronten esas facturas pero lo digo aquí y lo dijimos antes de ayer también en el congreso es intolerable

empresas de hecho además de todo ello esta

sobre incluir la situación de estos gastos energéticos desde una perspectiva de derechos de ciudadanía en la reforma que se abordará en este parlamento del sistema de garantía de ingresos porque esa es nuestra prioridad y la entendemos así que no haya ningún corte de suministro pero lo volveremos a decir basta ya y así

de pagar la cuenta de engordar la cuenta de resultados de iberdrola o de endesa me da igual cualquiera de ellas con el dinero de todas

de euros en el año dos mil quince y eso

anterior beneficios y por poner un ejemplo cercano de casa en el caso de iberdrola afirma que van a crecer hasta el año dos mil veinte a razón de un seis por ciento anual seis por ciento anual sobre dos mil cuatrocientos veintiuno millónes de euros

si se utilizase el cero coma doscientos ocho por ciento de esos beneficios a compensar las facturas que

tendríamos resuelto el problema concreto de la factura que no el problema global

y dónde queda la responsabilidad social corporativa que tanto anuncian por qué se permite esto

la impunidad de estas eléctricas con el continuo trasvase de políticos a los consejos de administración de las eléctricas el último conocido a principios de esta misma semana

y no es ni siquiera una cuestión de competencias que también lo es es una cuestión ideológica es una cuestión de compartir un esquema de gestión de lo público de la energía

y en madrid una gestión que camina siempre hacia la mercantilización de los servicios públicos y de los sectores estratégicos y de los derechos de la ciudadanía

y volviendo a nuestras competencias del parlamento vasco

instar al desarrollo de una normativa propia en euskadi en la que se establezca la obligación para las compañías eléctricas de comunicar los posibles cortes de suministro a las instituciones para que de esa manera las instituciones puedan actuar y evitar esos cortes

y se metía ayer la coletilla de mientras la ley lo permita la ley lo permite hay una ley en cataluña aprobada en dos mil quince que no está recurrida por el famoso tribunal constitucional que así lo dice nos felicitamos insisto por ello y además estaremos encima también del gobierno para que se ponga en marcha y le aplaudiremos cuando se ponga en marcha pero no menos cierto es que sin cambiar la legislación estatal

en euskadi y por lo que parece la legislación estatal no ha cambiado no ha cambiado en el día de ayer tras el acuerdo del partido popular y el partido socialista que dio lugar al real decreto ley siete barra dos mil dieciséis ese decreto ley no aborda esta situación no aborda una reforma integral del bono social y por eso tampoco ha sido posible incluirlo en esta transacción todo lo que

a legislar en esa materia insistiremos con nuestros grupos parlamentarios en que esas reformas se hagan y que se prohíban por ley una ley básica los cortes de suministro y digo yo que tan grave es prohibir en una ley

no es cierto que la constitución establece que la economía está supeditada al interés general y no es de interés general que no haya una sola persona en situación de verse abocada

dejo ahí las preguntas como así también lo dejamos en madrid por otra parte en este tema que se llama pobreza energética que en realidad no es más que un reflejo de ese fenómeno multidimensional que es la

existen disparidad de datos de informes de indicadores y que hay unas medidas buenas de la transacción es el establecimiento de indicadores

y cuantificarlas además de evaluar las políticas que se han puesto en marcha hasta ahora y además tomando en base dos directivas europeas que vienen muy a cuento

así lo hemos dicho que tras la aprobación de esta pnl no sea así

desde hace unos años y sabemos que hay que evaluarlos que hay que darles una vuelta porque precisamente las personas empobrecidas son aquellas a las que prioritariamente deberían ir encaminadas esos planes así lo hemos señalado en la transacción y así

por último y unido a lo que decía al principio de tratar los servicios energéticos desde una perspectiva de derechos de derechos de ciudadanía de derecho a tener energía de derecho a tenerla a un precio justo de derecho a que nunca se pueda cortar el suministro y el derecho por tanto a tener una vida y una vivienda digna

informado y asesorado sobre las tarifas las necesidades de cada hogar de forma que de una forma clara y sencilla la ciudadanía pueda optar entre la mejor tarifa que le corresponde porque ahora mismo no es así por eso introdujimos y saludamos también el acuerdo que hemos tenido

ese servicio de asesoramiento a la ciudadanía y para ir finalizando desde nuestro grupo saludamos y nos felicitamos por el acuerdo que hemos alcanzado en esta

acabarla con acuerdo y que luego estaremos atentos a que se pueda cumplir y además que si se pone en marcha en euskadi permitirá paliar la situación de las personas que sufren estas situaciones en euskadi pero seguiremos

de fondo y seguiremos reclamando por tanto que la energía la energía en primera vivienda que es necesaria para cualquier ser humano es un bien de primera necesidad que no podemos permitir que mientras haya ciudadanos y ciudadanas en euskadi que no pueden pagar sus facturas tengamos en la cuenta de resultados de iberdrola cifras de dos mil cuatrocientos veintiuno millónes

euros al día que no podemos seguir en manos de un oligopolio tolerado cuando no promovido

además debería ser el garante de un servicio esencial como es la energía como son los suministros vitales básicos que por tanto para finalizar necesitamos

como para el planeta un modelo energético impulsado por lo público con un claro impulso además de las energías renovables eskerrik asko

gracias señora presidenta buenos días señor lehendakari consejeros señorías tomo la palabra para

que si no recuerdo mal se titulaba medidas para garantizar los suministros vitales básicos para una vida digna y digo esto porque al final en lo que hemos acabado es hablando de pobreza energética porque entendemos que

energética y la energía es el bien común esencial e indispensable que permite a la ciudadanía tener una vida digna

en nuestra agenda aproximadamente desde el año dos mil nueve cuando aparece la directiva europea pero

décadas implantando medidas para su contención

sorprende determinadas indignaciones de última hora desde el grupo popular

no compartimos las medidas planteadas en su iniciativa por eso desde el grupo popular planteábamos una enmienda a la totalidad una enmienda muy clara muy limpia sin literatura de relleno por un lado instábamos

al gobierno vasco a que con carácter urgente apruebe la normativa específica para regular las ayudas que atienden las situaciones de pobreza energética en el país vasco

energética hay que decir que estas son dos iniciativas que recoge en la enmienda de transacción con mucha literatura y mucho adorno

no reconocer que estos son peticiones de esta cámara de hace más de dos años y lo que hacen en la enmienda de transacción es avalar la inacción del gobierno

lo que estaba haciendo que es nada porque aquí si no saben ustedes señores de elkarrekin podemos estamos en la política zen nada que pase el tiempo

les avalan que sigamos haciendo no quiere decir

nosotros teníamos un tercer punto en la enmienda de transacción en la que instábamos al gobierno de españa a que fruto del acuerdo con el resto de las fuerzas políticas del congreso

y que se actualicen los criterios de gestión este último punto ya se está ejecutando porque ya se aprobó el real decreto el martes

ley por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica real decreto ley por el que se incorpora a la ley del sector eléctrico

en situación de pobreza energética no es que con su enmienda

que no que esto es una declaración de intenciones que para que

se aprobó en el real decreto del martes al que ustedes no avalaron por cierto

este real decreto garantiza que ningún caso en españa ninguna persona va a tener un corte de luz por motivos de incapacidad para poder hacer frente a las facturas

un mecanismo para todo el territorio nacional en el momento que se produce un impago de suministro eléctrico la compañía tiene obligación de comunicarlo al usuario hecho que aunque parezca mentira no era obligación para las compañías

y ahora es obligación comunicarlo habrá muchos casos que serán por diversas circunstancias y que administrativamente

pero aquellas que son por incapacidad para pagar las facturas van directamente a los servicios sociales y es donde se les comunica

caso esté ya evaluado por los servicios sociales o no pero no me diga que el real decreto no vale para nada creo que son hechos muy importantes y no lo digo yo lo decía por ejemplo la portavoz del grupo socialista que es

estos aspectos en la ley por lo tanto creo que hay que reconocer a cada uno lo que corresponde señorías

incorpora avances importantes en el articulado de la ley del sector eléctrico en defensa del consumidor especialmente como les decía del consumidor más vulnerable además este real decreto forma parte de los pactos

autonómicos este acuerdo busca hacer partícipes a las comunidades del decreto ley para evitar cortes eléctricos en familias con pocos recursos en base a estos acuerdos se trazarán vías de coordinación para que junto con las eléctricas identificar

de garantizar el suministro es un hecho que en la conferencia de presidentes faltaron dos presidentes uno de ellos nuestro lehendakari pero los vascos no quedan fuera de los acuerdos porque el gobierno de españa representa a todos los españoles y por ende también a los vascos y catalanes que no estaban allí sus presidentes como decía los derechos

en esos acuerdos forman parte los vascos y los catalanes porque señorías porque falten dos garbanzos no vamos a dejar de hacer el cocido verdad

he visto la enmienda de transacción que han presentado y como les decía elkarrekin podemos renuncia a las peticiones que la iniciativa original planteaba y lo que se ha trasladado es a formar parte de la comparsa como les decía del pnv

haciendo lo que hacían que era la nada por lo tanto ahí estamos anclados es gracioso que el grupo nacionalistas vascos cuando va a madrid

se regodea de decir nosotros tenemos plenas competencias nosotros lo estamos haciendo todo no es necesario que ustedes aprueben nada porque nosotros somos competentes y entonces no es necesario que hagan y luego llegan aquí y resulta que en esta enmienda de transacción dicen por un lado que el gobierno vasco haga normativa

para paliar la pobreza energética y luego trasladan que en madrid se haga una ley de pobreza energética oiga que la hacemos aquí no por qué no la hacemos aquí

sea de verdad creo que es flojito el acuerdo que usted ha llegado de la iniciativa y de lo que planteaba

por un lado como les decía llevan dos años prometiendo la normativa que no llega y que ya veremos si llega ya veremos

de financiar suficientemente las partidas presupuestadas mediante las aes bueno ya sabemos cómo es por enésima vez cómo va

hasta cuándo llega cómo responden los ayuntamientos etcétera etcétera

desde el partido popular y desde el grupo popular en el ayuntamiento de vitoria ya se planteó una ayuda suplementaria para las situaciones de pobreza energética

a las personas en situación y ha llegado el grupo nacionalistas vascos y qué hace no ha quitado la ayuda pero la paga a los seis meses oiga a los seis meses

y ustedes en el ayuntamiento les apoyan no

están encantados oiga que a los seis meses les están pagando

que no solo es firmar iniciativas que también hay que tener criterio a la hora de ejecutar y qué se está haciendo cada uno y la señora rojo bueno

y está escrito por eso creo que son datos objetivos para luego firmar una enmienda

en esa tribuna y que era verdad que el gobierno vasco no lo hacía por lo tanto

objetivos pero mucho me temo que no tiene pinta de que esto se vaya a resolver pronto

existen diferentes posicionamientos al respecto una mirar para otro lado que es lo que se ha hecho hasta ahora dos plantear una solución de coyuntura que es lo que se está haciendo ahora o tres adoptar medidas estructurales que remedien situaciones dramáticas que puedan ser remediadas con solidaridad

legislación que proteja a los consumidores vulnerables considerando el suministro de la energía como un derecho social básico garantizando que los consumidores más vulnerables accedan a una tarifa social en función de sus ingresos y no del mercado en función en sus ingresos una tarifa social señora lópez de ocariz no bonos sociales

euros al año buen retiro a este hombre cuyas únicas declaraciones sobre el mundo de la energía se le recuerdan en galicia

y lo que dijo fue es probable que el fuel no toque la costa eso es

ezer entre todos habéis regalado

rescatado muchas veces a las empresas eléctricas a las empresas energéticas es bueno no olvidarse de algunas cosas para entender la estafa que se está produciendo hoy en día con los precios energéticos uno

moratoria nuclear mil novecientos ochenta y dos felipe gonzález con las empresas quebradas dos

de costes de transición a la competencia aznar mil novecientos noventa y siete y no devueltas

que decían que había que devolver ese dinero por cierto de aquella

y entre todas se llevaron más del doble que la suma de los casos gürtel noós palau de la música palma arena tarjetas black pujol malaya el caso de los ere

animadas a construir en pleno delirio de grandeza en los años dos mil cuatro

a pagar en treinta años en la factura del gas por no hacer caso a las organizaciones sociales que advertían del riesgo sísmico donde se quería construir la plataforma castor y para rematar

sin hacer una auditoria porque el oligopolio no quiere lo que nos duele en el fondo es que después de todo esto

y sus bicicletas verdes en plan bien pagá o a rendir pleitesía a sánchez galán cuando inaugura la torre de iberdrola un personaje que cobra cuarenta y dos mil euros al día

de una trama que nos roba a manos llenos y mientras la gente normal y corriente se echa otra mantita en su casa

y el gas y no lo pueden pagar y luego el problema eran las renovables y luego el problema era que no llueve señor rajoy

así que investigar y paliar la pobreza energética efectivamente bonos sociales y tarifas sociales sobre todo sí cosa que no se ha hecho en madrid programas de rehabilitación de vivienda por supuesto y hoy se aprobarán algunas medidas y estoy de acuerdo señora lópez de ocariz en que son insuficientes

sí gracias presidenta y buenos días o todos y a todas

escuchado lo escuchado mire señor otero no sé si es porque lleva poco en el parlamento pero pactar una enmienda e incendiar el debate precisamente con quien usted ha firmado la enmienda no sé si es lo más acertado para tener un debate

por qué cómo le podemos convencer es que tendría los

mire bildu tiene esa forma de hacer política olvidándose también un poco del pasado porque se le llena la boca hablando de felipe gonzález por cierto de quien

cuando el partido socialista trae la pobreza energética a este parlamento que lo hago yo misma ustedes votaban en contra ustedes la portavoz de su grupo

y que se hace adalid y protagonista de la solución no era la adecuada y votaban en contra y por el voto de eh bildu los señores del pnv ganaban la votación es que hay que mirar un poco la hemeroteca no solo del psoe de felipe gonzález

en un partido en el que forman parte diferentes fuerzas políticas hay que ser ajustar un poco la hemeroteca porque todos tenemos un poquito que tragar pero ustedes también y lo que le digo era cuando eh bildu era eh bildu votaban en contra por tanto en fin lecciones

que sea un poco de respeto al trabajo parlamentario de un grupo como el mío que quien trajo y puso la pobreza energética en la agenda política de esta país fuimos nosotros quien consiguió que el pnv aceptará una enmienda transaccional de presupuesto

fue el partido socialista de euskadi por lo tanto hombre al cesar lo que es del cesar y desde luego se ha firmado

en fin que no somos el enemigo en este punto al menos aunque le guste poco felipe gonzález algo habremos hecho bien digo yo y luego decirle al señor martínez

no se puede decir el titular de lo que firma el psoe con el pp no vale para nada en eso le tengo que dar la razón a la señora lópez de ocariz se ha leído el acuerdo si quiere le paso el resumen

esa que hablaba del hito histórico dice y hay tres medidas entre todas

son la adalides del movimiento a favor del cambio de hacer la ley

pero gracias a esa reforma se blindará a las familias en situación de pobreza energética le parece poco es que hasta hoy

segundo punto otra de las aportaciones que hicimos para el real decreto ley

que a nadie le cortarán la luz y el agua qué le parece poco también

vascas que se han podido acoger a la partida presupuestaria si les parece poco o mucho

con menores a cargo daba igual se cortaba y luego ya se preguntaba qué había sucedido

se pone en marcha medidas sectoriales que no solo tengan que ver con el ministerio que va a hacer la ley sino con todo porque es un tema transversal entonces no me parece justo ni de recibo decir que no vale para nada lo que le pasa un poco a elkarrekin podemos ya que el señor otero ha metido el debate que nos metamos entre nosotros que hemos firmado

o sea que no se puede venir aquí y creer que el mundo empieza con podemos todo el rato el congreso es que es verdad porque yo le agradezco la iniciativa que usted ha traído

me parece necesaria y me parece bien y por eso yo he formado parte del acuerdo pero que no es que usted nos ha venido aquí a contar como si aquí nunca hubiera pasado nada cómo que no se hacía nada

puntuales coyunturales estructurales cómo que no se hacía nada

una partida presupuestaria hace dos ejercicios presupuestarios y una doblada

no hacer nada es solamente hacer política de pancarta que se lo digo a usted siempre o sea se hacen muchas cosas que

puede ser pero no se puede decir que no se hace nada y más en este tema y no se puede hacer ese tipo de debates

utilizando pues las dificultades económicas que están pasando muchas familias aquí estamos para hacer política y para poner en marcha

pueden ayudar pero lo que no puede ser es que encima entre los que pactamos nos echamos las piedras en nuestro tejado para que la señora lópez de ocariz salga de rositas

y nos ha venido a dar aquí una lección de energía solidaridad y bueno derechos sociales a los ciudadanos

señora lópez de ocariz la señora lucio habló de hito histórico claro

porque a dieciséis de diciembre todas las iniciativas que habían ido al congreso y al senado

le puedo mandar un guión de todas habían sido tumbadas por el gobierno de mayoría absoluta del señor rajoy es que ni una habían salvado

que hayan venido al acuerdo pero lo que no puede ser es que ahora parece que ustedes son bueno los protagonistas

el partido socialista apoya políticas cuando entiende que eso va en beneficio de los ciudadanos pero señora lópez de ocariz si el partido popular para la desgracia de los ciudadanos

ustedes ni real decreto ley ni una medida ni hablar con las empresas suministradoras ni nada de nada y usted lo sabe perfectamente porque ustedes también son de los que cuando llegan determinados temas siempre votan en contra y entonces usted me dice cómo la señora rojo después de esos reproches sí sí

de seis puntos que lleva esta enmienda solo hay una que habla de que insta al gobierno

que garantizan que se sigan ayudando a las familias a través del convenio de cruz roja claro que sigan

porque nosotros antes estábamos en la oposición y hoy estamos en el gobierno y como estamos en el gobierno

que yo no me desdigo de nada de lo que dije hace un año ni hace dos ni hace ocho cuando traje el primer punto o sea la primera vez

es que aquí primero creo que debiéramos de huir de este tema y de la mayoría de protagonismos

tampoco voy a permitir es que se nos den lecciones unos porque dicen que no hacemos nada y son medidas puntuales o coyunturales otros

cuando algunos llevábamos años y años y años trabajando en esto otros porque como han perdido la mayoría absoluta a la fuerza ahorcan y han tenido que entrar al acuerdo con los socialistas porque tienen dificultades para esto del acuerdo y nosotros hemos entrado a este acuerdo

introduciendo medidas que realmente suponen soluciones pero lo que está claro es que si en este parlamento se habla de pobreza energética hay un partido que lo ha traído en más de veinte ocasiones

es porque el partido socialista lo ha pactado en dos ocasiones ya veremos por sus hechos les conoceréis dicen

ya veremos a qué acuerdos somos capaces de llegar pero tampoco nos olvidemos del pasado y pretendamos echar a los demás

mire aquí estamos en el parlamento vasco a ustedes que tanto les gusta hablar de las competencias y de euskadi

aquí estamos para arreglar el tema de la pobreza energética en euskadi nos hemos puesto de acuerdo con quienes verdaderamente conocen el campo y trabajan en el ámbito de la pobreza en este caso con cruz roja son ellos los que conocían quiénes eran los necesitados en este tema y son los que están actuando conocemos la memoria que han presentado respecto a la actuación que han hecho con dinero público

en la solución y dejar de ponernos nosotros palos en las ruedas creo que hoy es un día de celebración teniendo en cuenta que de cinco grupos parlamentarios

pero bueno que firmemos todos y que el partido nacionalista vasco firme el compromiso que ya está cumpliendo

estemos todo el rato incidiendo en aquello que nos separa y creo que lo que nos une hoy

yo también quiero que se haga una nueva ley del sector eléctrico yo también quiero que la electricidad sea un derecho ciudadano yo también quiero que sigamos trabajando para que la pobreza energética

pero también es justo reconocer las cosas cuando se hacen bien y este parlamento antes que muchos parlamentos puso sobre la mesa una partida presupuestaria

en porcentaje de población que ninguna comunidad autónoma y hay un acuerdo político amplísimo en aras a seguir con este tipo de política por lo tanto sigamos ahí

de cosas que no tienen nada que ver con esto intentando buscar enemigos donde no los hay por tanto el partido socialista obrero español ha firmado un real decreto ley con el partido popular en temas que blindan a las familias en situación de pobreza

y eso hasta ahora no se había conseguido por mucho que había parlamentarios de bildu en sus diferentes modos en todas las legislaturas

ha sido un fenómeno relativamente desconocido hoy como estamos

de este debate nadie pone en duda que exista aunque con sus problemas esta comunidad sea de las menos vulnerables

otra más de las consecuencias de esta crisis económica que ha disminuido en general los niveles de renta disponible de las personas principalmente aparece como una consecuencia de la carencia de recursos económicos suficientes pero también puede ser el resultado de malas condiciones objetivas de la vivienda

como dice el informe del ararteko presentado hace apenas un año

enmascarada en muchos casos dentro de situaciones más amplias de pobreza y precariedad va en la misma línea que otros estudios sobre pobreza energética de nuestro entorno donde se dice que la pobreza energética no es un fenómeno aislado sino una cara de la realidad multidimensional de la pobreza por lo tanto

en la que se ve en la obligación de dar respuestas a las diferentes manifestaciones

de la pobreza que se manifiestan especialmente entre los sectores más vulnerables que tenemos camino por recorrer respecto a la pobreza energética sí claro pero no es menor cierto que si miramos hacia atrás en el tiempo

tenemos mucho camino hecho gracias a nuestras instituciones el gobierno vasco por supuesto pero también diputaciones y ayuntamientos

y en esta sociedad se ha dado un sentido social que ha intentado en todo momento que nadie quedase atrás la pobreza no depende únicamente de ingresos económicos del acceso a los servicios en este momento por un lado yo quiero dar relevancia al acuerdo alcanzado no voy a entrar a juzgar

alguna de las posiciones que se han planteado

y quiero poner en valor que los cuatro grupos firmantes hayamos podido dejar de lado posturas maximalistas y priorizar el acuerdo creo que el tema que nos ocupa

una mayoría tan cualificada a marcar la dirección a seguir en los próximos años creo que la transaccional acordada atiende de una manera amplia y efectiva

con la iniciativa de hoy instamos al gobierno a que establezca un plan integral contra la pobreza energética desde una perspectiva integral le pedimos que investigue que analice

para detectar las manifestaciones del problema le solicitamos desde la convicción de que la pobreza energética merece atención específica a desarrollar las posibilidades

le solicitamos que siga atendiendo económicamente a quienes lo necesitan a que las personas más vulnerables puedan estar informadas acompañadas y protegidas en sus derechos le instamos a que regenere vivienda con parámetros de eficiencia y sostenibilidad pero también quiero resaltar en este momento que no empezamos de cero esta comunidad a pesar de que no cuenta con legislación específica en este ámbito es como he dicho antes de las menos vulnerables de nuestro entorno

cuando solo somos el cinco por ciento de población del estado cada una con sus particularidades

han ayudado y ayudan a paliar esta situación en dos mil quince el cuarenta y cuatro por ciento de los diez millónes destinados a ayudas de emergencia social a gastos derivados de situaciones de pobreza energética por eso recientemente hace apenas unos días se modificó y mejoró el decreto

que mantenemos un acuerdo con cruz roja para poder ayudar a quienes por la razón que sea no pueden acceder a estas medidas y otro tema que no es mejor se ha llegado a acuerdos con las compañías eléctricas para evitar los cortes de suministro a quienes no pueden hacer frente a los pagos

también la energética políticas de rehabilitación de las edificaciones existentes políticas de información y asesoramiento a los consumidores energéticos etcétera etcétera

sino el de vivienda el de desarrollo económico el ente vasco de la energía kontsumobide

ya hace tiempo que ayudan de diferentes maneras a paliar las causas y las consecuencias de este problema por todo ello hoy partimos de una posición privilegiada para acometer todas las mejoras que hagan falta

de las personas no se preocupe lo que hemos hecho en este acuerdo es que

estaban especificando que hay elementos que se hacen en euskadi es

todo eso y si todo lo que hemos acordado en esta proposición no de ley no se llega a cumplir nosotros estaremos en este parlamento para reclamárselo al gobierno

lo que falta además es la luz para calentar esos garbanzos

en su totalidad no aborda el decreto que se ha aprobado y además por decreto en el congreso que se ha dado el visto bueno

fuera a todas las personas que no están en los servicios sociales y deja fuera a todas las personas que no están en el bono social no incluye criterios de renta además el propio procedimiento aprobación primero por decreto y no en el parlamento deja fuera la posibilidad de aportaciones del resto de los grupos no incluye un procedimiento de prohibición de corte de luz

que es la construcción de una tipología de consumidor vulnerable y además no incluye el gas o el butano por ejemplo en ese decreto hicimos cinco preguntas

a recuperar la gestión de las hidroeléctricas desde el sector público dijo que no a derogar el impuesto del sol dijo que no y a bajar

esas son las respuestas del secretario general de su partido las aes evidentemente sabemos los problemas

financiar suficientemente las mismas por eso me parece sorprendente lo que dices e insisto si el gobierno no lo cumple estaremos aquí para reclamárselo

nos felicito a todos los grupos por haber llegado a ese acuerdo pero tampoco pasa nada y lo dije también

en este pleno por señalar diferencias que tenemos yo creo que hay que acordar

o en las medidas que podemos acordar en el día de hoy insisto no es mi programa de máximos no es nuestro programa de máximos ya nos gustaría pero sí hemos llegado a un acuerdo que lo ponemos en valor pero también hay que señalar

por eso también le reclamaba al partido socialista responsabilidad de haber aprobado

vasco de ese decreto que nos parece totalmente insuficiente y por eso votamos en contra creo que es necesario blindar a las familias que sufren esta pobreza evidentemente pero es que el decreto no señala no determina no

y creo que es un decreto tan fácil de hacer por decreto si quieren incluso le damos esa prerrogativa al gobierno sí lo quiere hacer

que se prohíban los cortes de suministros en primera vivienda no creo que sea tan difícil

que se prohíban los desahucios en primera vivienda creemos que en primera vivienda todo tiene que estar garantizado

a este parlamento y como no somos nuevos en política le voy a enseñar

presentó además una iniciativa que su grupo si no me equivoco votó a favor de una ley para prevenir la pobreza energética una ley

de precios concesión que se basará en la renta familiar del bono social consumo vital en cómputo mensual

un plan contra la pobreza energética una prioridad para los hogares afectados por pobreza energética para la reforma el iva reducido incluía además el gas la electricidad y el butano a nivel

reclamar la responsabilidad social de las empresas eso sí que lo incluía y el decreto que han aprobado

se lo decíamos por tanto nos felicitamos del acuerdo de hoy y estaremos encima para que se cumpla pero insisto no es suficiente y en el congreso nuestro grupo el de eh bildu el de psoe el del pp el del pnv el de unidos podemos tendremos que estar también para

sea efectivo porque hasta entonces no terminaremos de solucionar el problema de origen eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna euskal talde popularra lópez de ocariz andrea

señorías el objetivo de la política es buscar soluciones y no crear problemas en este caso el objetivo es atender a aquellos consumidores que no pueden atender el pago

son personas que se sitúan bajo el ámbito de los trabajadores sociales de los servicios sociales de las comunidades autónomas de las administraciones locales

puede y así lo ha hecho modificar la ley que no es fácil ley de energía este decreto ley modifica la ley en aspectos importantísimos para

el aviso previo la atención social el plazo de cuatro meses para su atención medidas estructurales solo se corrigen con legislación

sí los marca hay documentos que marcan los índices

a hacer en esta cámara una ley de pobreza energética

es que no lo han explicado y eso dice expresamente en uno de los puntos

yo digo bueno ustedes instan al gobierno de españa a que haga una ley de pobreza instan al gobierno vasco a que haga una normativa

no son capaces de explicar por qué en esa normativa no puede haber una ley de pobreza energética en esta comunidad autónoma decir señora rojo que el gobierno de españa viene años actuando en medidas por ejemplo además del bono social que ahora se ha modificado y yo creo que es mucho más riguroso y puede atender a muchísimas más personas que lo que atendía hasta ahora se define y se va a definir reglamentariamente el consumidor vulnerable o especialmente vulnerable o en circunstancias especiales sí se va a definir sabe usted que queda el reglamento que se está trabajando en los reglamentos por lo tanto sí y estamos hablando de un real decreto ley

ley por lo tanto hablamos de ley como decía se ha creado también un fondo nacional de eficiencia energética

lo que contribuye es a reducir el consumo energético de las familias y esto es un ahorro en energía

no decía nada de seguir garantizando yo le voy a decir la enmienda que usted firmó la que presentó con el grupo nacionalistas vascos de

seguir garantizándome ante las siguientes partidas presupuestarias y seguir favoreciendo seguir seguir

creo que tendrán que hacer un esfuerzo ímprobo para que este gobierno realmente se ponga las pilas porque es que no tiene voluntad no tiene voluntad ya lo ha demostrado y me da la impresión oído el portavoz del grupo nacionalistas vascos que le parece todo fantástico pues señores

del grupo que apoya al gobierno tienen un trabajo ímprobo por delante ímprobo nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea

no va a blindar a las familias que están en situación de pobreza energética eso

porque está pendiente de un desarrollo posterior reglamentario y lo que se ha dicho es que solamente se hará

de vulnerabilidad energética extrema al resto no al resto se le va a poder cortar a los cuatro meses y además de eso

en el decreto acerca del gas y el gas es el sesenta por ciento del calor y de los problemas energéticos en esta comunidad y en el país vale así que no va para nada por ahí se lo digo también a la señora lópez de ocariz que no soluciona nada por otra parte también me parece importante recordar que es verdad euskal herria bildu tiene algunos problemas para entrar en el debate de la pobreza energética porque y yo creo que usted lo ha representado muy bien porque precisamente

es que todo el tiempo lo estén llevando al lado del asistencialismo si el debate de la pobreza energética tiene algún interés es porque tiene dos elementos que son

de los productos energéticos a los que por cierto no han aludido en ningún momento

insisto en que porque eso pone nerviosas a algunas empresas con las que ustedes no se quieren meter entonces lo llevan todo al lado de la pobreza

y también lo critico porque cuando hay alguien que mete algo en un sentido estructural ustedes se encargan en dejarlo neutralizado es decir

las estrategias de emergencia se implante una perspectiva de derecho y protección y desde esta perspectiva

por ahí es por donde va nuestro discurso pero ustedes no han entrado a este discurso ustedes hablan de la cruz roja que no décimos que no haya que destinar ese dinero para la gente que se queda fuera de foco

pero en ningún momento estamos consiguiendo meter el no sé cómo decir encarrilar por dónde tiene que ir independientemente

que son importantes y están recogidas pero no se le está dando una solución estructural

grajales jauna comunidad de las menos vulnerables de nuestro entorno mesedez beste txanda badaukazu

tenemos mucho trabajo hecho en el tema de la pobreza energética

gracias presidenta otra vez efectivamente señor martínez tampoco es mi programa de máximos pero ni en esta proposición no de ley ni seguramente en la mayoría

me han votado mi iniciativa original la mía sola conmigo misma

y el pactar tiene lo que tiene que todos debemos dejar pues pelos en la gatera porque efectivamente si todos nos blindamos a lo nuestro pues complicado efectivamente si yo

tuviera que hacer su iniciativa con sus puntos a acordar y fuera lo que fuera aceptado en euskadi pues otra cosa sería efectivamente pero aquí venimos a acordar también

buscar soluciones y no crear problemas también hacer la política de lo posible

de la política y de la política de la gestión pues no se pueden llevar a cabo por tanto eso comparto con usted

porque usted hasta ha reconocido que el partido socialista votó una iniciativa en el congreso a la que usted se ha referido

que es que no acabamos de llegar al tema por tanto quiero decir que este tema lo defendemos cuando lo propone el partido socialista cuando en ese caso lo proponía otro partido y cuando hoy lo trae aquí elkarrekin podemos porque

sobre todo teniendo enfrente familias que en este caso no pueden pagar facturas luego

hemos renunciado a la ley de pobreza energética está bien que cuando se proponía antes de un acuerdo ustedes votaran en contra y ahora la piden también

porque hemos comprometido un nuevo marco regulador y es necesario ver cómo queda el marco regulador para luego poder empezar a ver qué cosas se pueden derivar de ahí porque usted sabe perfectamente que hay cosas que euskadi no puede hacer como por ejemplo intervenir en las tarifas eléctricas señor otero

se ha ido al debate que estaría muy bien que óscar matute lo lleve en el congreso de los diputados pero es que aquí venimos me parece bien que ustedes hablen de españa esa españa que tanto les horroriza pero de la que sobre hablan

pero que luego aquí solo hablan del congreso de los diputados del gobierno central

al señor urkullo como lehendakari y al gobierno en el que está mi partido que haga política para los ciudadanos vascos

también quiero que se puedan hacer cosas pero que no creemos

que no les digamos que vamos a hacer leyes que luego el gobierno de españa va a llevar a los tribunales porque nos metemos en competencias que no son nuestras

políticas en marcha eso es lo que creo que debiéramos de hacer

los demás nos quedamos casi en pájaros y flores mi pregunta es la siguiente para qué firma el acuerdo es que de toda su intervención primera y de la segunda

usted no se cree el acuerdo que yo quería más yo también soy más ambiciosa que lo que hemos pactado pero lo que tampoco voy a hacer es ante un acuerdo firmado

los que lo firman tumben el contenido del acuerdo si me preguntaran a mí muchas cosas diría sobre este tema y probablemente a todos los partidos

y si no se lo creía no haberlo firmado qué quiere que le diga si lo que usted cree que proponía era estructural coyuntural y solucionaba el mundo de la pobreza energética

natalia rojo no hubiera firmado por ejemplo no hubiera firmado

porque los acuerdos firmados representan mucho más que una firma en un momento puntual se firma un acuerdo que se cree defender y luego hay que venir a la tribuna y que parezca que uno se lo cree aunque sea y usted verdaderamente

porque a mí también me puede parecer poco pero quiero pedirle al gobierno vasco que dentro de sus competencias ponga en marcha posibles soluciones para una realidad concreta porque entre que definimos conceptos vamos a madrid y les pedimos que empiecen con la tarifa eléctrica

que se vayan de donde están y que no hagan lo que a usted le parece tan horrible que hacen las familias

nadie les hubiera ayudado a pagar la luz y el gas y señor martínez sí dice el acuerdo con el psoe que no se cortará la luz y el gas le puede un resumen que mi partido amablemente desde madrid me han mandado porque veo que los suyos le han omitido esa parte y luego otra cosa y termino presidenta el tema de la cruz roja no son cruz roja porque querer quitarnos responsabilidades

porque ellos reciben en sus puertas familias y ciudadanos que nunca van a los servicios sociales de base hay que descargar a los ayuntamientos en este tema porque

no se pueden acoger a esas ayudas que nuestro servicio público ya tiene pero necesitan un empujón para poder llegar a final de mes mi nombramiento a cruz roja es el reconocimiento del trabajo bien hecho en quien hace una memoria de lo que ha hecho

y lo que me parece es que lejos de pretender huir de la responsabilidades es hacerlo que uno tiene que hacer y reconocerle a cada uno lo que hace bien y cruz roja ha hecho un buenísimo trabajo

mahaiburu andrea señora lópez de ocariz pero para qué necesitamos una ley vasca de pobreza energética

la pobreza energética si se descuida la infantil la de las mujeres la de los jóvenes la de las personas mayores

después de veinte años de las políticas activas en materia de acción social que han puesto en marcha tanto este gobierno los anteriores las diputaciones los ayuntamientos

el cuarenta por ciento del gasto social de todo el estado se da solo

van a venir ustedes a darnos clases de cómo se combate la pobreza en fin el día que vea en madrid rgi el día que vea aes en madrid pues quizá

hoy creo que no toca creo que con lo que han hecho ustedes el martes están muy lejos de atacar a la pobreza de una manera estructural y a la energética concretamente

zer nolako balorea ematen diezun nadie lo he dicho antes todos hemos renunciado a maximalismos todos podríamos haber sido quizás más ambiciosos y a todos nos gustaría otra serie de cosas claro que nos gustaría incidir

pero es que ahora mismo no tenemos esa capacidad legal nos dice

el monopolio de la pureza en este parlamento lo tienen ustedes

hablemos también de la eficiencia pues hablaremos no sé si hablamos tanto como usted pero lo hacemos o no hace nada hoy el ente vasco de la energía o no hace nada el departamento de vivienda por la eficiencia energética

a traer lo antes posible ante esta cámara una ley de sostenibilidad energética

no estamos tanto detrás de la pancarta no estamos tanto detrás de la consigna pero hacemos día a día y termino nos decía defíname lo del entorno dos cosas le voy a decir a este respecto una

en materia de asuntos sociales compararme a ningún entorno de alrededor bien sea el español bien sea el europeo bien sea el francés no me importa

pues una vez más traemos al parlamento vasco el tema de la reapertura sí o no de garoña garoña ni se reabre ni debe servir como almacén nuclear y la decisión de hacerlo es política puramente política fue una decisión política de política energética y medioambiental

fue una decisión política decidir no prolongar los permisos más allá de la vida útil proyectada para las centrales y fue una decisión política abrir un proceso de transición energética

que contó no solo con el respaldo de una mayoría en el congreso de los diputados

en las juntas generales de álava y en el ayuntamiento de vitoria además de mayorías contaba con un respaldo social clamoroso pocas decisiones políticas se toman así y fue una decisión política del gobierno del partido popular desandar todo esto valiéndose en su día del esa mayoría absoluta que tuvo durante cuatro años y que parece ignorar que ya haya perdido

en un posible y futuro informe del consejo de seguridad nuclear vaya por delante esa posición porque podemos perdernos en esta tribuna en un debate técnico que espero que no suceda

nosotros no porque cuando el grupo socialista registró esta iniciativa en noviembre

no por repetir discusiones pasadas había factores nuevos que creíamos que lo hacían necesario una reapertura del expediente administrativo justificado por intereses ajenos a la política energética y medioambiental que está pendiente de dilucidarse

del congreso de los diputados con una mayoría de partidos que hemos llevado en nuestros programas electorales el compromiso de mantener cerradas las instalaciones una nueva composición en este parlamento con la incorporación de un nuevo grupo y que también llevábamos mayoritariamente en nuestro compromiso con los ciudadanos

por eso para reforzar la posición optamos por registrar esta propuesta para someter a debate lo hicimos desde la literalidad de lo que acordamos hace ahora un año y que supuso el respaldo unánime de la cámara con la excepción de un único parlamentario

que ahora no está aquí y pensamos que ahora esa unanimidad

pero creemos que no vemos que no porque no estamos en vísperas de elecciones municipales en las que un alcalde y a la vez parlamentario busca su reelección

en las que tener en cuenta una cuestión que ha movilizado tanto a la ciudad alavesa en toda su pluralidad

de exigencia de cierre ya no estamos en víspera de elecciones es verdad pero algunos seguimos comprometidos con lo que nos comprometimos con los ciudadanos es su decisión y en su turno les corresponderá explicar si van a votar sí o no

en el proceso de enmiendas es verdad que algunas formaciones han introducido determinados puntos

y lo que habíamos conseguido era un posicionamiento que pudiera ser compartido por todos y sin peros eso era lo que queríamos hacer valer y lo más importante en este parlamento uniera de nuevo su voz en insistir en el no a garoña

que es una cuestión política pero no tanto por la politización

que ya en anteriores ocasiones hemos dicho que debiera de cambiarse este perfil por un perfil profesional lo hemos dicho y lo repetimos es política porque diga lo que diga ese órgano y diga lo que diga ese informe la competencia última sobre el expediente administrativo es del gobierno de españa y se tomará en un consejo de ministros obviamente

riesgos el gobierno salvo irresponsabilidad supina debe zanjar esta cuestión pero aunque la conclusión del consejo fuera que no hay riesgos

tenemos claro que apostamos por un modelo energético que se aleje de la producción nuclear porque informes técnicos de la reapertura vamos a encontrar y sobre todo si los buscamos en estos últimos días hemos podido leer en diversos medios algunos artículos expertos en la materia que defienden la reapertura que hablan de una plena seguridad

lo hemos podido leer pero es que eso ya lo habíamos leído antes pero es que ya hemos decidido otra cosa políticamente y lo preocupante es que en algunas de esas opiniones se desliza incluso la idea de que la factura eléctrica sería más barata si se mantuvieran esas instalaciones y eso es tanto como mentir al ciudadano que puede leer la noticia porque todos sabemos que no es así que garoña

de riesgo sobre cosas que ningún experto puede eludir sobre los residuos no es necesario para la producción energética y su funcionamiento no afecta a lo que pagan los consumidores

nos deslizan que las energías renovables son más caras son más caras sobre todo porque hay un gobierno en españa el gobierno de rajoy que castiga fiscalmente a quienes deciden producir su propia energía porque si se apostara con decisión por esas fuentes

de aliviar las facturas domésticas lo que quisiéramos

a apostar con decisión por esas energías naturales que apostara por la investigación y la innovación para abaratar la forma de obtener la energía de forma más limpia que facilitara a los consumidores mecanismos que les hagan ser conscientes de la procedencia de la energía que utilizan para ser colaboradores en esta estrategia haría falta en definitiva en principio otro gobierno en españa un gobierno con intención de afrontar el futuro pero seguimos con un gobierno anclado en el pasado

es mucho menor esfuerzo que innovar a ese gobierno le queremos decir desde el parlamento vasco que no tome una decisión ajena a los intereses y voluntad de los ciudadanos que vuelque su empeño en ofrecer alternativas de empleo y desarrollo a la comarca que se va a ver afectada por el cierre definitivo de la actividad de garoña que no intente contraponer el efecto indudable que tiene esa decisión

con la demanda que estamos haciendo porque enfrentar a ciudadanos entre ellos es una estrategia que trae consecuencias indeseables pedimos al gobierno de españa que no vuelva al decretazo que es lo que más le gusta sino por convicción sí porque sus decisiones puedan ser revertidas por una mayoría distinta en el congreso

un cambio en la forma de funcionar en el consejo de seguridad nuclear si estas demandas son desatendidas entonces seguiremos defendiendo ante todas las instancias

el cierre definitivo de garoña mi partido ya lo ha anunciado no ha sido el único partido que lo ha hecho y hoy lo compartimos con el resto de grupos que se quieran sumar nada más muchas gracias

necesitamos mantener garoña abierta y la respuesta es evidente para nada la energía nuclear en españa ya es prescindible el sistema eléctrico peninsular tiene una capacidad de producir electricidad que triplica las necesidades máximas que se pueden registrar en el día de mayor demanda del año

si se clausurasen el resto de nucleares del país algo que unidos podemos ha demandado recientemente en el congreso de los diputados se ha demostrado este invierno que el único país que ha sufrido cortes de luz generalizados en toda europa

con mayor dependencia nuclear de la unión europea es decir francia además el coste de la energía nuclear como ha dicho la señora rojo es superior

si queremos que el precio de la electricidad se abarate de una vez por todas deberíamos apostar por las energías limpias y no por las energías del pasado entonces

tres respuestas fundamentales la primera es para crear un precedente garoña no es el objetivo sino la excusa es la excusa porque si se prorroga garoña detrás vendrán las demás centrales nucleares del estado y no hay que perder de vista que el parque nuclear español

pero claro de esta manera se convierte a la ciudadanía burgalesa alavesa y a la vasca en general en conejillos de indias de las estrategias energéticas globales de las empresas

es para exprimir el negocio al máximo garoña como todos sabemos ya está amortizada esto significa que puede producir electricidad a un precio muy inferior al del coste real entre otras razones puede hacerlo porque el coste de la gestión de residuos radiactivos lo pagamos entre toda la ciudadanía

en estas condiciones además entra en juego la perversa subasta eléctrica diseñada en su día

esto significa que el negocio para nuclenor es redondo producirá casi gratis y venderá caro tan caro como le sea posible aunque luego

a las que ya nos hemos referido en el punto anterior porque una cosa son las causas y otras las consecuencias y ahora estamos en las causas y tengamos en cuenta además que las reformas necesarias que se han publicitado en los medios de comunicación para la reapertura de garoña implican una inversión entre ciento cincuenta y doscientos millónes de euros

en unos diez o doce años háganse entonces una idea de qué orden han de ser los beneficios que nuclenor pretende conseguir en ese plazo de tiempo para amortizar dicha inversión

es que si se concede la prórroga y no se llegase a ejecutar las empresas propietarias tendrán derecho posiblemente a pedir indemnizaciones millónarias por el lucro cesante

un negocio redondo y un precedente para los próximos cierres de nucleares previstos en el estado la tercera razón por la que se quiere mantener abierta garoña es para poder mantener operativo el almacén temporal de residuos nucleares que ahora mismo existe en el recinto de la central porque a falta de un almacén centralizado en toda españa la solución del gobierno central es dejar los residuos en las propias centrales y esta decisión en sí misma no solo comporta la prórroga de la vida del almacén

a los que estará sometida toda la ciudadanía del valle del ebro desde tobalina hasta tortosa

quién quiere mantener abierta garoña y la respuesta parece evidente garoña se reabrirá por iniciativa de las empresas propietarias pero no solo por esa iniciativa estas empresas no solo se han limitado a presentar la solicitud sino que han movido los hilos necesarios y han tocado las puertas giratorias

para conseguir su objetivo porque el informe publicado la semana pasada por el consejo de seguridad nuclear no es una novedad todo el mundo sabía que iba a ser favorable se sabía desde que el consejo de seguridad nuclear dejó de ser un organismo independiente

y mientras se mantenga la politización del consejo de seguridad nuclear ya no hay jaula para los leones los técnicos que eran domadores

así las cosas quién puede cerrar garoña de forma definitiva bien en la proposición no de ley que se presenta hoy

para que actúe e impida la reapertura pero no tenemos ninguna confianza en ese resultado no va a ser el gobierno central quien la cierre

por lo tanto la única salida que le queda a este país si quiere que la central se cierre es presionar a las empresas propietarias iberdrola y endesa para que renuncien voluntariamente a la reapertura

la primera sería que algunos partidos representados en esta cámara aprovechasen por una vez sus puertas giratorias en beneficio de la ciudadanía y no al revés por ejemplo que el partido popular hablase con ángel acebes que está en iberdrola o con josé maría aznar que está en endesa y les pidiesen efectivamente

que se cumpla la petición de la ciudadanía de que se cierre la central nuclear pero no lo harán

y es que este parlamento tome de una vez por todas cartas en el asunto y asuma el liderazgo por el cierre

nunca ha querido asumir y que se estudien todas las vías jurídicas y legales para recurrir la reapertura ante las instancias estatales y europeas que correspondan

segura y sin amenazas en tercer lugar

porque en última instancia el único lenguaje que entiende la empresa capitalista es la de que el negocio se ha terminado en conclusión y para ir terminando quiero recalcar desde elkarrekin podemos que no tiene sentido mantener abierta una central nuclear de casi cincuenta años que es gemela a la de fukushima y a otras centrales que en bélgica ya han sido clausuradas

y que esta central además necesita profundas reformas para volver a ser operativa pero quiero recalcar que no para ser segura porque no es lo mismo ser operativa que ser segura en segundo lugar

de unas compañías eléctricas privadas a la seguridad colectiva de las personas y del medio ambiente y esto es inadmisible azkenik

y no ha habido muchos cambios excepto que el paso del tiempo hace que tengamos ya cuatro años de parón de garoña y también que tengamos encima de nuestras cabezas

haga un informe favorable a la reapertura de garoña aunque esa amenaza ha estado siempre pendiente en el tema de garoña vamos a empezar con los datos económicos aunque nosotros haremos mucho hincapié en la seguridad nosotros queremos que se cierre garoña

y creemos que esto es el máximo argumento que podemos esgrimir a la hora de pedir un cierre definitivo de garoña pero también hay datos económicos

las empresas propietarias siguen ganando en sus balances

los accionistas en proporción directa en los beneficios siguen con unos dividendos mayores año tras año pese al cierre de garoña e incluso

el aumento de las tarifas eléctricas hablaba de que es posible que hubiera origen que era el cierre temporal de tres centrales nucleares francesas es decir ni se acordó

para hablar de que garoña pudiera tener cierta parte de culpa en el incremento de las tarifas culpa que no tiene porque todos sabemos que aporta

nadie lo ha echado de menos vamos ya a la seguridad el ser humano

ha inventado mucha tecnología muchas industrias muchos aparatos y siempre que inventaba algo

es decir si un día explotaba una factoría química se podía saber más o menos el radio de acción y si un día

se podía más o menos decir incluso cuántas víctimas podría haber y cuál podría ser el radio de acción de esa la consecuencia de la explosión

hay que reconocer que estamos todavía es decir en los albores al ser humano creo la energía nuclear pero se le escapó el control de esa energía nuclear y tenemos ejemplos que a mí gustaría poner que son los de siempre que los hemos oído en este parlamento más de una vez en ucrania en el año mil novecientos ochenta y seis hace treinta y uno años hubo un accidente nuclear

han pasado treinta años y a los rusos se les acaba de ocurrir insisto treinta años después de que la zona quedara completamente devastada la única solución posible y ha sido

y esconder lo que hay abajo siendo conscientes de que

que por el subsuelo o por las corrientes subterráneas de agua se siga contaminando es decir que

esconder durante un siglo dicen que van a estar cien años en el que hay que tapar esa central nuclear y sin saber tampoco sí a la vuelta de cien años

eso indica que la seguridad nuclear ni en rusia ni en ningún país del mundo es completa ni fukushima hace seis años accidente nuclear que todos tenemos creo que muy reciente en la retina de nuestros ojos porque fueron imágenes impresionantes han pasado seis años y tampoco la

miles de hectáreas devastadas decenas de miles de personas que han tenido que irse a vivir a treinta kilómetros de su residencia habitual y que no saben nunca sí van a poder volver a su casa o van a tener que tardar varías décadas en intentarlo esto es lo que nosotros ponemos como ejemplo no hay seguridad nuclear

el reactor nuclear y dijo que tenía una vida de cuarenta años útiles y sin embargo ahora hay un ministerio

por arte de birlibirloque prolongar esos cuarenta años en quince años más

que queremos añadir quince años más a la vida útil de un reactor nuclear que estaba ya censado que tenía su duración en el tiempo

de garoña y con los datos de la seguridad que nos toca más de cerca a los alaveses

en el valle del alto ebro que es donde esta garoña los vientos dominantes tienen una dirección que es nor nordeste es decir que apuntan directamente a gasteiz y también tienen una velocidad intermedia que puede ser poco más o menos de veinte kilómetros por hora

de lo que puede ser un mundo muy malo pero tenemos ya chernóbil y fukushima con lo cual

estadísticamente normal un día en la que el viento tuviera una dirección normal y una orientación normal hubiera un accidente nuclear en garoña pues yo soy de letras pero es una regla de tres sencilla

podríamos tener la contaminación o la nube tóxica encima de gasteiz en dos horas dos horas y media todos sabemos que una ciudad de más de doscientos mil habitantes

en tan corto espacio de tiempo pero además hay que añadir que antes de que esa nube tóxica llegara

de cuarenta mil burgaleses que viven en miranda de ebro y por encima de las cabezas

frontera natural con el norte de burgos y con el río ebro

demostrado que sin ser catastrofistas hay un peligro grandísimo de la posible reapertura de garoña un peligro para

sí ellos quieren para gasteiz y para araba lo que vimos en fukushima y lo que vimos en chernóbil yo pienso que reteniendo un poco aquellas imágenes ya es suficiente como para decir que no podemos asumir ni correr ese riesgo

de un material que evidentemente según su fabricante estaba completamente acabado

siempre hemos tenido en este parlamento con el asunto de garoña sesenta y cuatro votos a favor y once en contra hasta que un día javier maroto convenció a sus compañeros de bancada que también el pp en euskadi podía votar a favor del cierre de garoña

yo pienso que es importante que en el día de hoy hubiera una mayoría absoluta como hicieron las juntas administrativas los ayuntamientos alaveses las juntas generales de álava

el cien por ciento del parlamento vasco pide el cierre definitivo de garoña

recordarles algo así como una responsabilidad ética del voto es decir si por lo que sea garoña se reabre y si ojala

yo pienso que los que han votado a favor de la prórroga de garoña tendrían cierta responsabilidad ante la población

que se trata de una amenaza sobre todo muy cercana besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

acuerdo y crítica vamos un poco a las dos cosas pero bueno yo

acordamos cosas y está bien las ponemos en valor eso se pone en valor a través del voto positivo

sea conveniente analizar legebiltzar honetan

el incendio se representa a través de un tetraedro en ese tetraedro

y una energía de activación es decir algo que dé un calor de inicio para que el proceso se mantenga necesitamos también una serie de reacciones en cadena

sobre una sobre dos sobre tres o sobre cuatro variables si actuamos sobre más variables tendremos más probabilidades de éxito sute potentziala dagoenean

suaren oinarrizko teoria ondo funtzionatzen duela por una parte tenemos unas compañías

aportan el combustible por otro lado tenemos un gobierno pronuclear que le da el aire y tenemos un consejo de seguridad nuclear politizado

que aporta los informes favorables es decir ponen la energía de activación

tenemos un sistema energético obsoleto sucio y peligroso que viene a ser la reacción en cadena pues bien este es el escenario y siendo serios deberíamos actuar sobre todas las patas del problema para que garoña

y no solamente garoña en la medida en que euskal herria es un territorio sin centrales nucleares debemos empujar para que como hizo

se plantee de una vez por todas el cierre y desmantelamiento del parque

lo que no podemos hacer y lamentablemente es lo que ha venido sucediendo es quedarnos en nuestras proposiciones con un solo o unos pocos ámbitos de acción

al gobierno en forma de instancias para que no conceda el permiso de reapertura estaremos haciendo una presión muy débil porque el gobierno nos puede hacer caso o no

y para no estar en esta situación hubiera sido interesante no permitir el acceso del partido popular al gobierno del estado verdad partido socialista o mejor aún hubiera estado bien no ser cautivos de la presión del oligopolio y cerrarla cuando tuvieron ocasión verdad partido socialista o hubiera estado bien tener esto como prioridad

o más hubiera estado bien no apoyar la ley de sostenibilidad energética

verdad partidos popular socialista y nacionalista tenemos que poner el foco

de acuerdo también en el consejo de seguridad nuclear porque ya vale de tomarnos el pelo el consejo de seguridad nuclear es un órgano títere de los intereses del partido del gobierno

merece un cese fulminante lo que nos cuesta más entender es por qué algunos partidos no tienen intención

hay que tocar también a las empresas pronucleares y al modelo energético hemos debatido en el punto anterior sobre las razones y creo que es obvio

con las empresas energéticas dificulta enormemente hacer fuerza en este aspecto y explica

pero en realidad sería la fórmula más eficaz porque el verdadero origen del problema quienes aportan el combustible para este incendio son y endesa que están utilizando la batalla de garoña no solo para reabrir garoña sino para prolongar la agonía nuclear

a penalizar su comportamiento van a seguir dando por buenas nuestras declaraciones bienintencionadas por eso

y explicarles que estamos dispuestos a desenchufarnos si no cambian de actitud así actuaríamos sobre el combustible de este incendio pero para eso hay que estar en disposición de que se nos enfaden y nos dejen de subvencionar posiciones de privilegio verdad partidos popular y nacionalista y obviamente nada como dar pasos en un modelo energético renovable descentralizado sin nucleares

férreo de las empresas oligopólicas sobre el mercado para eso hay que estar dispuestos a un poquito más y sinceramente hoy por hoy no vemos

que estemos de acuerdo con lo que se va a aprobar gaurko proposamenak nahiz eta guk nahi bezain sendoa ez izan ohiko deklarazioez

gracias presidenta señorías consejera

siete debates y lo primero que hizo la señora rojo fue presentar la proposición no de ley sobre garoña de nuevo en esta legislatura

y los pronunciamientos son habituales en relación con garoña y nosotros consideramos innecesario por reiterativo repetitivo esta nueva petición de posicionamiento por parte de la cámara los mismos argumentos

pero hoy lo que hay sobre la mesa es una cuestión técnica en relación con informes en relación con cuestiones técnicas básicamente

siete debates y resoluciones en esta cámara entre dos mil trece y dos mil dieciséis completando todas las posibilidades de instancia y de petición

catorce de marzo de dos mil trece pnl seis de junio de dos mil trece moción

de dos mil quince moción diecinueve de noviembre de dos mil quince

veinticinco de febrero de dos mil dieciséis pnl calcada

menos de un año a la de hoy calcada a la de hoy además pidiendo todo tipo de actuaciones e instando a un gran número de instituciones promoviendo o planteando

recursos estudio de recursos informes jurídicos comisiones etcétera no hay nada nuevo en los planteamientos de esta iniciativa y eso ya lo hemos hablado y nada es nada

es algo que aún no se ha producido y no es el dictamen del pleno del consejo de seguridad nuclear sería la aceptación por la empresa de las condiciones técnicas requeridas estamos hablando

y la resolución definitiva de autorización del gobierno de españa algo que no se ha producido algo que en este momento no consta ni teóricamente se ha completado lo que eso sí se está completando un procedimiento exigido administrativo pero

estamos no ha cambiado absolutamente nada en este parlamento ya se ha instado a los ministerios o a ministros al gobierno de españa al gobierno vasco a nuclenor

al consejo de seguridad nuclear en muchas en reiteradas ocasiones a hacer lo mismo que estamos haciendo hoy y es que también estamos en un proceso y es que el gobierno de españa ya habrá tomado nota de estos pronunciamientos en fechas anteriores no hay variación aún en relación con esas cuestiones y hoy estamos vuelvo a decir ante un procedimiento administrativo

está hoy no se puede cercenar unilateralmente es un procedimiento administrativo que está en curso y no se puede cercenar unilateralmente

ya que si no se hace así se abriría probablemente una vía judicial y contenciosa pues nada deseable y que seguramente tampoco tampoco

a las pretensiones defendidas por estas iniciativas que constantemente nos plantea

yo no defiendo a garoña ni voy a defender a garoña la empresa nuclenor

y en este momento los está ejerciendo en base a la legislación vigente nos guste o no y esa pretensión se encuentra en un trámite administrativo preceptivo

ese es el asunto fundamental y bueno no se puede impedir al gobierno de españa

esta situación se está estudiando donde se tiene que estudiar para luego tomar la decisión que tenga que tomar

pronunciado en esta cámara un nuevo posicionamiento o pronunciamiento no resuelve nada y además en esta reiteración en esta repetición se desvirtúa precisamente por eso por reiterativo por repetitivo los pronunciamientos anteriores yo creo que me da la sensación y además es un consejo que yo creo que tiene fundamento y sentido yo creo que retirar la iniciativa y presentarla cuando de verdad haya novedades sobre este tema pero no hay novedades señora rojo no hay novedades preséntela cuando haya novedades sobre este tema porque los pronunciamientos de hoy son los mismos de los de hace un año y de los de hace dos años en relación con esta cuestión

lo que tiene que ver con los informes que tienen que hacer los servicios técnicos de esta cámara o los servicios técnicos del gobierno vasco

en el gobierno vasco no hace falta el pronunciamiento de esta cámara

que procedan a lo que dice el último punto de esta proposición no de ley y en la cámara y

la mesa del parlamento vasco los cuatro firmantes de esta proposición no de ley están en la mesa del parlamento vasco no hace falta una proposición no de ley era la única novedad de la pnl la única todo lo demás ya lo hemos debatido señora rojo

y lo que es tan repetitivo y tan reiterativo se desvirtúa
señora rojo muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

le guste a usted no le guste le aburran no le aburran pueden cambiar de portavoz y como usted está aburrido pues que lo haga otro

usted sabe que el partido popular quiere volver a hablar de garoña está esperando un informe

de la decisión política escondiéndose en una decisión técnica punto y se acabó esa es la situación en la que nos encontramos entonces en fin si a usted le gusta la iniciativa bien y si no también por tanto no diga que no hay novedades porque hay novedades

pero la política es como es y en poco tiempo cambiaron las cosas y ustedes votaban aquí de una forma cuando les convenía cuando el señor maroto se jugaba

por decirle algo claro que los argumentos son los mismos solo faltaba pero la verdad es que ustedes no dicen lo mismo siempre

que cuando el señor maroto estaba en el parlamento por lo tanto

lo mismo y luego decirle señor otero es verdad veo que con usted eso de pactar y el tema de las críticas bueno pues está bien vamos a hacerlo usted hablaba que bueno señores del grupo socialista

y no de reojo mirar yo miro para atrás de lo que hizo el psoe en el tema de garoña y efectivamente

seguramente y no estaríamos probablemente como estamos hoy se lo reconozco

hay momentos en los que nos equivocamos y probablemente lo podíamos haber hecho mejor y probablemente las decisiones se podían haber tomado de otra manera yo sí miro para atrás

no nos venga aquí a contar como que acaba de llegar a la vida política de este país usted también puede mirar para atrás y no me piense mal y vaya donde cree usted que le estoy hablando que también se lo podría decir pero no lo voy a utilizar hoy pero es que bildu ha gobernado en gipuzkoa

igual oligopolios txikis en euskadi también ha habido en gipuzkoa

y se les dio trece millónes de euros por no hacer nada nada trece millónes de euros del dinero público de los guipuzcoanos que se podía haber utilizado para hacer informes de renovables para pobreza energética en muchos ayuntamientos para muchas cosas se podría haber utilizado pero de eso ustedes no hablan

pero eso también si es que algunos dicen que cuidamos unas empresas bildu cuidaba a otras empresas en gipuzkoa y qué ha pasado a diferencia

pues que han llegado a los tribunales y les han tumbado el convenio y ahora qué

por tanto cuando se le quiere acusar a determinados partidos de cuidar a unas empresas en intereses no se de qué

pues por favor miren para atrás porque ustedes mire en esto podemos

han gestionado han gobernado y han hecho cosas que en fin que si yo las tuviera en mi historial permanecería callada por tanto aquí

aquí cada uno tiene que aguantar su vela y de la misma forma que yo reconozco que hay cosas que nosotros podíamos hacer mejor

desde luego si alguien no es perfecto es bildu y miremos para atrás pero señor otero no de reojo yo digo abiertamente que en el tema de la central de garoña

sí efectivamente pero lo que no puede ser es que ahora ustedes vengan aquí como si fueran los defensores de todo y nunca hubieran cometido ningún error

trece millónes de euros son trece millónes de euros dinero público sí o no dinero público se lo han tumbado los tribunales sí o no se lo han tumbado ya ahora qué

nada porque hay otros que trabajan le puede gustar más a usted menos

pero ustedes han dado parte de las arcas públicas guipuzcoanas por estar abro comillas tocándose los pies

o no señores de eh bildu es que aquí todos tenemos que escuchar

ha vuelto a incendiar el debate y ha vuelto a buscar el enemigo donde era un aliado en la firma que hay abajo del documento

señor otero no sé si vamos a seguir en esta trayectoria va a ser muy difícil y termino presidenta y sabe lo que pasa que en esta cámara

o acabaremos votando cada uno lo nuestro y no haremos nada y cuando salgamos a la calle ese pueblo que les gusta a ustedes hablar como la voz del pueblo nos van a pedir explicaciones y con razón por tanto no incendiemos

lo que no hace falta incendiar porque si no hay incendio no hace falta apagarlo eskerrik asko rojo andrea elkarrekin podemos taldearen ordezkaria becerra jauna zurea da hitza

bueno para empezar tengo que decir que coincido con el análisis que ha hecho

y actuar sobre todas las variables que afectan a la posible reapertura de garoña y en este caso

y eso es verdad pero la unanimidad siempre se ha producido hacía el gobierno central fundamentalmente

es cierto que tiene la última decisión y en eso no coincido con el señor barrio esto no es una cuestión meramente técnica es cierto que la empresa tiene un derecho

a pedir la reapertura pero también es verdad que el informe del consejo de seguridad nuclear no es vinculante es decir la última decisión le corresponde al gobierno central y eso es importante

rojo incluye intereses empresariales legítimos posiblemente pero incluye esos intereses empresariales

y son unos intereses que mezclan muchas veces la política y la empresa y bueno es cierto que no me voy a meter no voy a profundizar en el tema de la puertas giratorias un poco por la elegancia de que si hemos firmado conjuntamente

proposición no de ley no voy a profundizar en este tema pero los intereses empresariales y los intereses políticos están íntimamente entremezclados y tienen mucho que ver con el hecho de que

ha dicho el señor ramírez escudero que las nucleares son un riesgo claro

por lo menos en este país y antes es bueno que ahora por fin empecemos a dar la razón

y ha dicho una cosa que es importante exijamos responsabilidades también es verdad pero no se las exijamos solamente al gobierno central

a todas aquellas personas y organismos que pudiendo hacer algo no lo han hecho

al gobierno vasco o incluirá a los partidos políticos yo he mencionado antes que por una vez convendría que aquellos partidos políticos que tienen representación en los consejos de administración de ciertas empresas

dado en llamar las puertas giratorias por una vez en beneficio de la ciudadanía porque de verdad su partido no puede hacer nada más que lo que ha hecho para cerrar garoña

en este sentido porque hemos firmado esta proposición no de ley pero dejo aquí esa pregunta para la que responda porque usted sí

a quienes gobierna pero hay otros intereses en este parlamento de gente que no está dando esas cuentas porque el partido popular

que dice defender a la ciudadanía alavesa demuéstrenlo de una vez por todas no solamente votando aquí en el parlamento no solamente votando en el parlamento sino moviendo todos los hilos que ustedes saben que pueden mover tanto en el gobierno central como en las empresas que están pidiendo la reapertura para que esto no sea así

si existe esa reiteración señor barrio en las veces que este tema ha llegado esta cámara es porque esa preocupación social existe existe y es obligación de los partidos que estamos aquí de los grupos que estamos aquí darle respuesta a esa preocupación social porque si luego pasa algo

no solamente con los votos sino con nuestras actuaciones que por una vez anteponemos la seguridad de la ciudadanía vasca a los intereses empresariales y ahí entonces

cuélguense si quieren la medalla pero hagan por favor lo que les corresponde hacer también de cara a la ciudadanía muchas gracias

que no había nada nuevo que no ha habido cambios que llevamos siete

hacer la reversión de sus argumentos ustedes votaron que no a garoña hace unos meses y no ha cambiado nada por qué ahora parece que

de que no hay ningún cambio es bueno para decirles para recordarles que si con los mismos argumentos hace un año o año y medio votaron que no a garoña y si como usted dice no ha habido ningún tipo de cambio argumentación en que ustedes podrían volver a mantener ese voto de no a garoña hay dos teorías una esperar a que los acontecimientos sucedan y otro adelantarse yo estoy de acuerdo con la iniciativa porque podríamos esperar a que el consejo de seguridad nuclear diga algo pero corremos el riesgo de que

de que se tome una decisión y teniendo cierto olfato de cuál puede ser la decisión nos adelantemos

en contra de una posible reapertura de garoña ustedes que van tanto aquí

a ustedes sus militantes de los pueblos cercanos al límite con burgos no les dicen que tiene cierto miedo al funcionamiento de la central nuclear todos los militantes de pp de álava están a favor de la reapertura yo

a doscientos kilómetros puede que estuviéramos hablando de otra cosa pero es que estamos hablando de una cercanía

y ustedes que defienden tanto los intereses de álava creo que este es un interés primordial de la seguridad de álava creo que tienen una oportunidad de oro hoy para sumarse al resto de los votos y para que mañana insisto y repito

el parlamento vasco el cien por ciento el pleno vota en contra de una posible

yo no sé si nos vamos a llevar bien o no no sé si vamos a acordar o no pero desde luego yo que si tengo de lo que sí tengo claro es que yo no voy a hacer juego sucio y lo que sí tengo claro

es juego sucio quiero decir sí y lo tengo muy claro cuando yo estoy hablando de pobreza energética y hablo de los desmanes

y la modificación de los precios y cómo los poderes públicos han trasvasado miles de millónes de euros estoy hablando del punto que nos ha traído aquí y cuando estoy hablando

estoy hablando de eso me parece que eso es bastante diferente y es decir yo lo que he hecho es hablar del historial del partido socialista en esos puntos que estamos tratando hoy saltar de ahí

responsabilidades sobre la historia o el histórico

me parece que es juego sucio político y cambiar el foco del punto que estamos tratando con lo cual yo no lo voy a hacer

los trece millónes de euros que pagó en indemnización euskal herria bildu en gipuzkoa para la paralización de una incineradora

que no hacía falta se han visto multiplicados esta misma semana

el señor asensio hipotecando a todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas para los próximos treinta y dos años una incineradora que no va a hacer falta solo lo traigo porque usted ha traído la incineradora

y vuelvo con el histórico quince de febrero de dos mil once zapatero presidente

vota una enmienda del senado que retira el límite de cuarenta años de vida de las centrales nucleares votos a favor partido popular

partido nacionalista vasco y convergencia y unió al salir

declara que había quedado específicamente fuera de ese acuerdo específicamente fuera garoña convergencia y unió interpretaba que no

no le quedaba claro y por terminar

creemos insistimos en que es importante para ejercer una presión verdadera para el cierre de garoña y el resto de centrales nucleares ir metiendo

a las empresas que están intentando que se alargue y en ese sentido yo creo que

de las iniciativas que se puedan aprobar o no aquí euskal herria bildu está haciendo un trabajo interesante en este sentido está intentando poner coto al prácticamente monopolio que tenían

las licitaciones del alumbrado público en los contratos de los ayuntamientos

y también para terminar ya que de tres o cuatro intervenciones que he tenido tres o cuatro respuestas he tenido ya acerca de las pancartas y para dejarlo claro de una vez porque si no me parece que nos vamos a pasar cuatro años hablando de las pancartas

yo soy una persona que defiende las pancartas no hace falta que ustedes me lo recuerden porque creo que evidentemente se pueden cambiar las cosas a mejor desde

han sido completamente necesarias para hacer la presión necesaria para que pudieran cambiar las cosas así que por supuesto

no tengo ninguna duda si tengo que elegir entre la puerta giratoria hacia la pancarta que es de donde yo vengo o la puerta giratoria

de cualquier empresa energética oligopólica pues está claro cuál es mi elección lo que me gustaría es que me respondieran si sería la elección
de todos y cada uno y cada una de ustedes muchas gracias eskerrik asko otero jauna

gracias presidenta señora rojo mire la que no

prolongó la vida útil de garoña cuando podía haber el partido socialista haber cerrado garoña no lo hizo

varios años más y podría haberla cerrado ese es el elemento fundamental nos hubiese evitado esa decisión en aquel momento

todos estos debates nos hubiese evitado todo este tiempo que hemos empleado así como en la comisión técnica del csn en hablar de este tema y la verdad es que hay una cosa que es sorprendente ustedes

del gobierno de españa en relación con esta cuestión ustedes dan por hecho un planteamiento del gobierno de españa el gobierno de españa lo único que hace es que se cumpla la ley

en relación con la normativa en relación con las leyes que se aplican y en relación con esos pasos procedimentales y administrativos a los que la empresa tiene derecho a ajustarse

que no hay nada nuevo que los debates repetitivos reiterativos se desvirtúan por sí solos que hay que esperar a que haya algo nuevo y en cualquier caso cuando lo haya

sobre decisiones sobre planteamientos sobre figuras jurídicas administrativas políticas o legales pero ahora no hay nada nuevo por eso mismo yo creo que se desvirtúa esa cuestión y señor becerra el informe del csn

si el csn pide el cierre claro que es vinculante en cualquier caso siempre será preceptivo y el gobierno lo tendrá que tener en cuenta en relación con las cuestiones técnicas pero el csn es vinculante usted ha dicho que no es vinculante es vinculante

de la central en fin mire nosotros nos vamos a abstener

ya nos hemos pronunciado en esta cámara muchas veces y yo creo que damos un toque de atención con este planteamiento en relación con el uso de estos debates no estos debates reiterados repetitivos que en este momento

incluso sus propios planteamientos y su propia argumentación en relación con nosotros en relación con la situación objetiva es la misma

de entender un esfuerzo político que se hizo en esta cámara y lo que quieren es

de entender lo que es el parlamentarismo pues bien algunas posiciones en un momento determinado concreto

para seguir instalados en la bronca y yo por cierto

dos una pues que sigue el procedimiento que se inició en agosto del dos mil catorce y sigue instalado y el consejo de seguridad nuclear como nuclenor tiene derecho pues está haciendo el análisis y segundo las noticias que

y yo qué leí a sánchez galán once cuatro dos mil dieciséis sánchez galán

el cierre de la central nuclear de garoña lo dijo sánchez galán lo leí cinco días abc diario norte lo dijo él yo creo que es el elemento fundamental

garoña de nuevo que lo va a hacer seguramente esta es la primera

algo nuevo sobre lo que debatir porque si no ese planteamiento desvirtúa enrarece

a traer un tema de la que sí es competencia esta cámara y de la que sí es competente

nosotros hemos planteado hace ya mes y medio se ve hoy la urgente necesidad de que este gobierno se plantee en serio la creación

pues hablábamos de los dos planes de la legislatura pasada que no se ha hecho balance de ninguno de ellos que los datos

que seguíamos a remolque del crecimiento de españa dábamos en la iniciativa algunos datos por ejemplo que la tasa de ocupación en el país vasco en el dos mil ocho era del cincuenta y tres por ciento y hoy es del cuarenta y ocho

o que el crecimiento del empleo la creación de empleo en españa en el último año

estos son datos voy a dar alguno más para que se vea cuál es la situación del país vasco claro los jóvenes

hablo de menos de treinta años la tasa de actividad en el año dos mil cinco en el país vasco era del sesenta coma siete

la tasa de ocupación era del cincuenta y cuatro por ciento hoy es del treinta y siete por ciento y el paro era el diez por ciento

el veintiocho por ciento el veintisiete coma nueve por ciento tenemos menos población ocupada

la población total en el dos mil dieciséis al cierre es menor

que en el dos mil catorce que era menor que en el dos mil trece cada vez somos menos cada vez somos menos la tasa de actividad en españa es casi dos puntos y medio por encima de la del país vasco eso sí la tasa de paro la tenemos más baja y voy a leer

bildu y podemos y nosotros nuestra iniciativa cuando nosotros estamos hablando de creación de empleo estamos hablando en el sector privado no estamos hablando

eso es muy fácil siempre y cuando haya alguien que lo pague pero es que el empleo público se paga desde los impuestos que se generan desde el sector privado y el problema no lo tenemos en el sector público

que antes de la crisis no ha bajado el empleo público en el país vasco

lo que ha bajado es el empleo privado y la calidad del empleo privado

y voy a leer algunos titulares del último año de los últimos meses al país vasco le sobran universitarios le faltan obreros cualificados estudio de laboral kutxa

más de ciento nueve mil jóvenes vascos se fueron desde dos mil pero este era de hace dos años son más

tres veces más que los extremeños este titular salió en el deia euskadi se sitúa en dos mil dieciséis a la cola de españa en bajada de paro y creación de empleo esto son titulares que han salido en la prensa en los últimos meses y que evidentemente no los ha desmentido nadie porque evidentemente responden a datos ciertos

hoy tenemos dos datos pues que no son tampoco buenos el paro sube

yo no sé si es normal que suba casi el doble que en españa de la tasa pero bueno es un mes de enero y es un dato coyuntural

que dice que kutxabank va a prejubilar a trescientos personas

nuestra proposición no de ley y hay un informe

por la upv el informe laboral de euskadi que tenía un titular bueno o el titular que se daba era bueno en principio porque decía más o menos que hemos recuperado la tasa de empleo industrial y antes de la crisis claro el dato malo es que sí tenemos el mismo porcentaje pero tenemos

lo cual quiere decir que hemos destruido más de cien mil puestos de trabajo es decir tener el mismo porcentaje pero

aunque el titular sea bueno pero lo que hay debajo no es bueno y los siguientes datos que nos dan

tampoco sean especialmente buenos envejece la población envejecen los parados y prácticamente nos dicen que los jóvenes de veinticinco años están ausentes del mercado laboral esto es lo que nos dice este informe que se hizo público ayer

denunciando esto que está pasando en el país vasco y cómo nuestros jóvenes los más preparados se van fuera hay diferentes fórmulas para rebajar la tasa de paro una es se crea empleo y la gente encuentro trabajo otra es

encuentra trabajo y no está apuntada al paro claro

al inicio de esta legislatura de llegar a la tasa del paro por debajo del diez por ciento

claro con que la mitad de los que se jubilen solo la mitad solo se amorticen la mitad de los puestos de trabajo es decir y entre la mitad a trabajar

qué estamos viendo con las prejubilaciones y las jubilaciones

pudieran acceder jóvenes pero no está ocurriendo así y no está siendo así y ese es el problema que nosotros vemos nosotros denunciamos en la legislatura pasada la falta de inversión del gobierno

también había ayudas a los emprendedores pero luego en la ejecución se iba a cero y se recortó la ayuda a la conciliación de la vida

yo tengo aquí los datos del gobierno de ejecución presupuestaria de inversiones y de gastos año dos mil diez

inversiones mil quinientos millónes de euros gasto corriente

año dos mil quince gasto corriente

cien millónes más inversiones setecientos cincuenta millónes la mitad que en el año

hace cinco años el gobierno vasco invierte de verdad lo que ejecuta no lo que nos trae en los presupuestos la mitad

el gasto corriente ha subido la inversión real y la inversión que crea empleo esa se ha reducido a la mitad bien nosotros

el discurso del lehendakari de que en esta legislatura la prioridad es el empleo de que en esta legislatura la prioridad porque en la pasada no lo ha sido y a los datos nos remitimos es el problema de población y de envejecimiento que tenemos y vamos a creerle y vamos a hacer un esfuerzo en llegar a un acuerdo o impulsar un acuerdo y hemos llegado a una transacción con los grupos que apoyan al gobierno para que esta vez

no para criticarlos porque los datos ya los tenemos los datos de paro y empleo ya los tenemos

pero debe de servir para ver en qué cosas hay que mejorar de cara al nuevo plan yo entiendo todos queremos que se creen empleos y que sean de calidad

en los plazos que hemos firmado nos trae para hacer el balance de los planes de la legislatura pasada y después nos viene un plan de verdad con medidas de verdad para que las ayudas a la conciliación sean reales y no se recorten como se han recortado estos últimos cuatro años para que las inversiones de verdad se hagan

se ejecuten y se les vea a los emprendedores y cuando haya ayudas a la inversión

y por lo tanto por eso hay dos cosas que nosotros hemos planteado en nuestra iniciativa y en la transaccional que hemos llegado con ustedes el balance del plan anterior y el nuevo plano cuya prioridad debe ser

la creación de empleo para esos grupos que evidentemente todos sabemos que son los más desfavorecidos en este momento

son los jóvenes también los mayores parados de larga duración y las mujeres que son las paganas sobre todo en la calidad del empleo pero especialmente los jóvenes sobre todo

estarán por la labor de tener una sociedad que funcione

fuera del país vasco como está ocurriendo ahora con miles y miles de ellos

esto no lo vamos a ver cuando venga el plan digo las prioridades del gobierno las vamos a ver cuando venga el presupuesto

dentro de un mes o cuando lo considere conveniente será cuando nosotros veamos si de verdad

y el gobierno vasco su prioridad es la creación de empleo estable y de calidad eskerrik asko damborenea jauna

egun on denoi en euskadi hemos conocido los datos a finales de enero

dos mil más que en diciembre debemos sumar a estas desde luego aquellas que necesitando empleo no constan oficialmente como tales demandantes de empleo

grave nos encontramos también una realidad en la que el empleo tiene unas condiciones cada vez más precarias temporalidad precariedad parcialidad creo que en esta cámara también ya hemos tenido oportunidad de decirlo según lanbide

fueron temporales casi el cuarenta por ciento a tiempo parcial y además son las mujeres las que más lo sufren

estos contratos los últimos planes de empleo del gobierno vasco no han modificado esta realidad

por lo tanto se hace necesario en nuestra opinión un análisis en profundidad de dichos planes y también en nuestra opinión una nueva política de empleo basada sí en nuestra opinión

en la calidad del empleo y también en el apoyo a las pequeñas empresas y a los autónomos hoy lo que tratamos aquí es en origen una iniciativa del partido popular para crear un plan interinstitucional de empleo con actuaciones concretas

estable con medidas específicas para los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral

desde nuestro punto de vista toda una contradicción ya que quien hoy manifiesta en esta cámara tanta preocupación por el empleo estable y por determinados colectivos es precisamente el partido que ha aprobado la mayoría de las reformas que han provocado y acentuado la actual precariedad y temporalidad

responsable en última instancia de la desaparición de muchos convenios colectivos responsable de que la juventud tenga que emigrar al igual que ya lo hicieron nuestros abuelos al menos los míos la verdad es que desde nuestro grupo

que hace el partido popular al plantear la iniciativa original poner a españa como ejemplo en cuestión de políticas de empleo no nos parece lo más oportuno en estos momentos ustedes ni siquiera se sonrojan al decirlo y nosotros lo que décimos es que la situación tanto de estado como en euskadi a la clase trabajadora

ese ejemplo y esa justificación la mayoría de las medidas y reformas que ustedes han impulsado nos han traído la situación actual aquí y en el conjunto de españa

y cronificación de la pobreza hemos sufrido una pérdida de derechos individuales y colectivos con las reformas laborales también la primera del partido socialista y sobre todo

a los trabajadores cuando han pretendido defender sus derechos hoy todavía

encausados por participar en movilizaciones y huelgas por lo tanto su propuesta nos plantea de origen serias dudas sobre lo que pretende y sobre en qué tipo de plan

la salida de la crisis que entendemos que pretende el partido popular

el señor rosell ayer mismo si no me equivoco cuando ha venido a decir que se puede crear empleo y que hay que crear empleo pero que ese empleo no podrá ser de calidad creemos que ese es el trasfondo de la cuestión y que ahí

por eso ya le hemos manifestado al gobierno vasco que para nosotros en cuestión de política de empleo

el que sea eso es importante y nosotros estamos de acuerdo pero para nosotros con la situación actual no es suficiente

en nuestra enmienda unos pilares que para nosotros sí son importantes o fundamentales y entendemos que no los comparta el partido popular no esperamos desde luego otra cosa

nosotros entendemos que el sector público es en sí mismo o puede ser en sí mismo la mejor herramienta para la creación de empleo de calidad y desde el gobierno vasco además se tiene la capacidad para hacerlo estamos hablando además de unos empleo cuya finalidad son la de garantizar los servicios públicos para la población

sanidad educación servicios sociales dependencia movilidad pero también el sector público puede generar otros tipos de empleo y no solo se financia mediante los impuestos de los empleos privados en segundo lugar nosotros planteamos también que es necesario redistribuir y racionalizar el empleo que ya existe

en una sociedad cada vez más automatizada el reparto del empleo es imprescindible para garantizar un empleo a todas las personas creemos que cualquier plan de empleo hoy en día debe abordar medidas del reparto de trabajo no puede ser además

cuando hay mujeres y hombres que quieren trabajar y no encuentran las jornadas de trabajo cada vez son más largas en este país y en el conjunto del estado consideramos que las administraciones públicas pueden liderar la implantación de programas de reparto del trabajo porque la dimensión en sus plantillas

consideramos que la calidad del empleo como ya he dicho tiene que ser fundamental a la hora de elaborar planes de empleo no voy a volver a repetir la opinión que tiene el señor rosell y que creo que ustedes comparten y me gustaría que el gobierno no compartiese y en manera especial me gustaría que el partido socialista y obrero lo compartiese

es una de las consecuencias de las últimas reformas laborales la realidad es que hoy hay personas que necesitan varios trabajos para llegar a fin de mes muchas personas

la rgi para nosotros por lo tanto la política de empleo tiene que garantizar que el empleo sea de calidad esto nos parece fundamental

sí el apoyo a las pequeñas empresas privadas nosotros no estamos proponiendo sustituir el conjunto de los empleos privados del país por empleo público

empresas y a los autónomos para que estén efectivamente en condiciones de crear

es donde mayor dificultad tenemos las y los trabajadores para defender

para nuestro grupo para nuestra coalición eso son pilares en los que se debería basar un plan de empleo en la iniciativa presentada por el partido popular

que apoyan al gobierno se nos plantea en nuestra opinión una iniciativa más genérica y por lo tanto en estos momentos de gravedad insuficiente todos los grupos compartimos que los planes de empleo recojan medidas dirigidas a los colectivos con mayores dificultades jóvenes mayores de cuarenta y cinco años mujeres personas dependientes

duración y añadiríamos también personas con diversidad funcional la diferencia de fondo

y la transacción a la que hemos llegado los grupos a la izquierda de la cámara no es esa

la estimulación del sector privado esperando que las empresas y el mercado hagan el resto o si por el contrario apostamos por una política de empleo que apueste por construir un potente tronco público capaz de articular y ser tractor para un país con empleo de calidad y servicios públicos potentes para la ciudadanía además consideramos fundamental a la hora de presentar planes de empleo la participación de los agentes sociales

aparecen por ningún lado para nuestro grupo el diálogo con los sindicatos o todos los agentes pero de manera especial con los sindicatos debería ser piedra angular

como para la lucha contra el desempleo para finalizar en nuestra transacción también

hablamos del balance del plan de empleo dos mil catorce dos mil dieciséis nosotros estamos de acuerdo que hay que discutirlo pensamos que

si el modelo es útil para lo que dice defender o si por el contrario es necesario ya

también la propuesta que ustedes finalmente presentan transaccionada indica habla de medidas para promover y favorecer la empleabilidad para nosotros esto es del todo reduccionista ya que la empleabilidad aunque importante

no proporciona ni trabajo ni empleo ni derechos ni vida digna a las personas es fundamental la atención a los colectivos más vulnerables y con mayores dificultades de inserción

sea con derechos de calidad estable y segura de lo contrario se perpetuará perpetuaremos un modelo que es el que se pretende es

el mercado laboral ya lo ha dicho el señor rosell un modelo donde quizás reduzcamos las tasas de desempleo

con empleo precario para que alguien aumente sus tasas de beneficio eskerrik asko

guztioi el empleo es el eje básico de la actuación política del conjunto del gobierno esa es la primera frase del texto del acuerdo

con esa frase no solo dejamos claro una declaración de intenciones sino que más allá de todo eso adquirimos un compromiso con la sociedad vasca

al reto de crear empleo estable y de calidad empleo duradero y en condiciones dignas que constituya

sólido pero ante todo un paso firme que nos acerque a una sociedad igualitaria un compromiso que queda referenciado como prioridad a través del programa marco de empleo cuya aprobación está prevista para el primer semestre del presente año tal y como quedaba reflejado en nuestro propio acuerdo de gobierno reducir las tasas de paro

en aquellos colectivos que tienen mayores dificultades de inserción laboral como son los jóvenes los mayores de cuarenta y cinco años y parados de larga duración las mujeres o las personas dependientes un programa marco amplio con medidas tangibles y concretas un programa que afectará también a varios departamentos del propio gobierno que no solo se ciñe

más allá de todo eso en esa misma línea la colaboración interinstitucional resulta fundamental y muy especialmente en todo lo que se refiere

a nuestros ciudadanos y ciudadanas por eso los socialistas vascos reivindicamos el papel de los ayuntamientos de las diputaciones y de las agencias

la situación económica de algunas comarcas y determinadas poblaciones en euskadi

planes específicos de actuación para corregir y eliminar los desequilibrios con respecto al conjunto de nuestra comunidad autónoma adquirimos ese compromiso de nuestro propio programa electoral pero también a través del acuerdo de gobierno como decía antes suscrito entre el partido socialista y el partido nacionalista vasco es algo que está

en ese acuerdo de gobierno y son planes que abordarán cada situación de manera específica

de la actividad económica constituirán la piedra angular de los mismos pero como decía anteriormente no será la única piedra angular no será la única cuestión que se trate

programa marco de empleo en esta cuestión de hecho no partimos de cero y cabe recordar que durante la pasada legislatura y en lo que se refiere a la colaboración interinstitucional se acometieron iniciativas en base a condiciones establecidas por la propia unión europea dentro del denominado mapa de ayudas regionales una iniciativa que venía del marco europeo pero que incluso fue asumida dentro de esa

ánimo de colaboración interinstitucional por el gobierno vasco a todas luces a resultado insuficiente necesitamos por tanto un enfoque mucho más amplio que desde la intervención y colaboración interinstitucional desde el liderazgo del propio gobierno vasco que ponga un mayor énfasis y dé carácter prioritario a la creación de empleo entendemos precisamente que la herramienta más adecuada se encuentra en ese programa marco un programa que debe fijar

efectivamente la creación de empleo pero también la implantación de medidas concretas que favorezcan la creación de empleo juvenil

de la mujer a la actividad económica y laboral o el impulso a la formación para el empleo o el apoyo al emprendizaje o el apoyo a las pymes y a las personas autónomas

un programa marco que de forma complementaria recogerá los planes de reactivación económica en el ámbito de la inversión de la innovación de la internacionalización

y energético y también de la regeneración urbana de zonas deprimidas en base a un modelo de

sostenible un programa en el que sin duda la colaboración

será de vital importancia este gobierno tiene por delante una ardua tarea que dará sus frutos a lo largo del presente semestre tal y como venía reflejado

de gobierno momento por tanto para el análisis para el trabajo y por supuesto para aportar desde la objetividad desde el espíritu constructivo

medidas efectivas que materialicen y hagan posible la consecución de los objetivos que nos hemos planteado en este sentido creo sencillo el acuerdo con el partido popular ya que en el fondo de la cuestión estábamos de acuerdo como creo que también en algunos puntos estamos de acuerdo con los grupos eh bildu

para poner en práctica como decía esas herramientas y ese programa marco que consideramos tan necesario beraz gai honetan

berraktibazioa eta iraunkortasuna da por lo tanto el gobierno vasco y los grupos que los sustentan están preocupados y ocupados en sentar los mimbres poner las condiciones para crear más y mejor empleo el compromiso del gobierno vasco para esta legislatura

es reducir la tasa de paro por debajo del diez por ciento tal y como manifestó la consejera artolazabal en la comparecencia en la que se explicaron las líneas de actuación principales de su departamento

que el empleo y la reactivación económica son las dos caras de una misma moneda están indisolublemente unidas por eso el compromiso del gobierno de presentar un programa marco de empleo y reactivación económica en el primer semestre del dos mil diecisiete liderado

el citado programa marco contendrá un plan específico de empleo que incluirá medidas a favor del empleo juvenil por el cual todos los grupos hemos demostrado

la inserción laboral a través de los planes locales y comarcales de empleo como

el emprendimiento el apoyo a las pymes y a las personas autónomas como también mencionaba el señor hernández la consolidación del comercio local y programa renove en la edificación especialmente intensivos en la creación de empleo de forma complementaria

en el programa marco se recogerán los planes de reactivación económica en el ámbito de la inversión la innovación

asimismo estamos convencidos y convencidas que la política pública de empleo y reactivación debe ser acompañada e impulsada

consolidando un marco permanente de negociación entre agentes económicos y sociales y reforzando un sistema vasco de relaciones laborales creo que el señor hernández también hacía mención a esto

es necesario que rememos todos y todas en la misma dirección que unamos fuerzas para conseguir más y mejor empleo y reducir la tasa de desempleo estoy convencida que todos los grupos compartimos esta afirmación aunque quizás discrepemos en las medidas a implementar o en el camino a recorrer la meta es la misma conseguir más y mejor empleo respecto a la iniciativa original me sorprendió la solicitud de pedir al gobierno vasco un plan interinstitucional de empleo donde ni tan siquiera se mencionaba con qué otras instituciones se había de trabajar para su elaboración tendría que acordarlo con el gobierno de nafarroa con el de la rioja con el del estado

con el de francia o quizá con todos ellos a la vez de verdad piensa señor damborenea que la fórmula era efectiva podría entender que se instara a que fuera interdepartamental pero no veo clara la referencia al resto de instituciones sinceramente que dificultaría su elaboración implementación control y valoración posterior de los resultados insisto compartimos y defendemos plenamente la colaboración interinstitucional pero cada institución tiene sus competencias propias

la estrategia vasca de empleo dos mil veinte sale de la comisión interdepartamental de la mesa de diálogo social de la participación de más de cincuenta agentes además de diferentes departamentos y otras entidades del gobierno

con el resto de instituciones y agentes y así lo continuará haciendo eusko jaurlaritzak erakunde eta eragile ezberdinen ikuspuntuak kontutan eduki behar ditu

para finalizar al representante del partido popular su voluntad de diálogo ha sido fácil llegar

de dos puntos en el primero se pide la valoración del plan de empleo anterior dos mil catorce dos mil dieciséis valoración que nos parece fundamental para poder seguir avanzando para poder acertar en las medidas a implementar en el próximo

y el segundo punto se insta al gobierno a que presente

programa que servirá de paraguas al plan de empleo que asimismo se presentará a esta cámara en la correspondiente comisión

egoera gordina eta oso kezkagarria las subcontrataciones son cada vez más frecuentes tanto en el ámbito privado como en el público lo que a menudo supone un empeoramiento de las condiciones laborales la negociación colectiva está bloqueada

pero también en la negociación colectiva del ámbito público está bloqueada esta negociación y ahí de medio patronal nuestro mercado laboral presenta un alto nivel de precariedad ya se ha mencionado antes que estamos en un noventa y tres por ciento de contratos que se firmaron que eran temporales pero es que la tasa de temporalidad del propio gobierno vasco es de entorno al treinta y cuatro por ciento arlo publikoan

eta prekarietatea ere oso handia dela no comparto lo planteado en este sentido por el señor damborenea

un sesenta por ciento de las personas desempleadas no tiene ningún tipo de protección eta gurera langile pobreen fenomenoa ere iritsi da askotan aipatu dut

izan y consideramos que esa petición del partido popular se queda un poco corta porque si las cosas no cambian señor damborenea tras lo escuchado en las diferentes comparecencias y al lehendakari urkullu pues probablemente estaremos ante un plan definido en términos y en principios

plan horretan aipatzen zen esa voluntad de diálogo entre esos principios

la negociación permanente con los agentes y se dice

señor damborenea y necesitamos unas garantías de que ese plan

como habíamos marcado un poco en esa transaccional que hemos firmado con podemos

de ese diagnóstico compartido y con la participación de todas y todos y en un debate público porque la propuesta que nosotros hemos transaccionado con podemos reúne esas condiciones de contemplar la evaluación de garantizar la discusión política

de todos los agentes vamos a posicionarnos en esa posición que hemos comentado mila esker eskerrik asko kortajarena

lo de los mantras y repetirlos mucho está muy bien pero luego hay que a la hora de discutirlos o debatirlos hay que poder mantenerlos usted nos habla de la temporalidad que es mayor es mayor en el país vasco

que antes de la crisis y la ley es la misma y cuando en españa los datos son mejores que aquí también nos tenemos que preguntar

hemos tenido en estos cuatro años aparte de que el gobierno evidentemente

unos sindicatos y tenemos unos sindicatos que en fin alguno de ellos no ha colaborado gran cosa en acuerdos parece que las cosas cambian y que parece que vamos a ir a mejor ojalá ojalá pero tenemos nuestro hecho diferencial con la misma ley para todo el mundo yo mire esto de las reformas laborales cada vez que hay una reforma laboral todo el mundo se queja yo me acuerdo la primera que le hizo felipe gonzález y también todo el mundo se quejó

claro en un sistema económico de autarquía de autarquía con empresas que eran monopolios

entramos en europa competimos y nos compiten por lo tanto hay que adecuarse a la situación

usted nos habla del empleo del sector público y tiene que ser el tronco de lo público

yo se lo he dicho antes todo el empleo público se paga con lo que viene del privado todo

que hoy hay más empleos públicos en el país vasco que antes de la crisis

en peores condiciones porque los públicos no los empleados públicos en este país

privilegiados entonces cuando ustedes cogen y me plantean aquí que lo importante es el empleo público pues no sé quién está o vive un poco más

el reparto del trabajo es una fórmula que ya lo oímos en el año noventa y seis en la crisis de los noventa con felipe gonzález y el socialismo hay que repartir el trabajo

cuando a alguien no se le ocurre nada para crear empleo o favorecer la creación de empleo pues viene con esas cosas

y como sacudirle al pp es deporte nacional la acusación es que había mucho mileurista

el drama era que había gente que cobraba mil euros verdad

yo no sé qué obsesión tiene usted con el señor rosell le diré que no era mi candidato preferido de los que se presentaron en la ceoe pero lo que diga el señor rosell él sabrá lo que dice y porqué lo dice

usted me dice el apoyo a las pequeñas empresas y yo le tengo que decir que cualquiera que hable con los empresarios con confebask no con el señor rosell o con las patronales alavesa vizcaína y guipuzcoana y dirán que el problema es que las empresas son demasiado pequeñas

para crecer es que la normativa que hay hoy es que como una empresa pase de pequeña a mediana o de mediana a grande pues le viene el palo desde todos los aspectos fiscal laboral económico y entonces no crecen

de abaratar costes no laborales sino costes y poder salir fuera y vender más fuera y en algún momento habrá que plantearse eso yo

se lo comento y desde luego los agentes sociales por supuesto que son necesarios a la hora de elaborar un plan pero especialmente los empresarios porque el empleo

o mediante sociedades pero son los empresarios y evidentemente hay que tenerlos en cuenta o sea los empleos no se van a crear

o porque digamos que hay que crear empleo no esto no funciona así es la sociedad civil la que tiene que funcionar y nosotros lo que tenemos que ayudar a que funcione

señora amaia arregi plan interinstitucional con quién hombre en esta cámara cuando hemos hablado de planes interinstitucionales siempre nos hemos referido a gobierno vasco o diputaciones forales

incluso en los ayuntamientos y en esta materia de empleo las diputaciones forales

las diputaciones forales tienen dos competencias muy importantes una es la fiscal

en españa se incrementa el tres por ciento y en el país vasco el uno coma cuarenta y seis la mitad la mitad que en españa sí que se incremente es bueno pero lo que pasa es que en el resto se está incrementando el doble

iremos a peor cada vez seremos menos pero podremos llegar a rebajar la tasa
de paro del diez por ciento amaitzen joan damborenea jauna podremos rebajarla

dentro de cuatro años habrán ciento veinte mil jubilados más habrán quedado ciento veinte mil puestos de trabajo

que solo con que la mitad se ocupen pues habremos

jóvenes del paro sin hacer gran cosa ahora como sociedad qué seremos menos gente más mayores

eskerrik asko bueno yo creo que el señor damborenea ha explicado

lo que piensa su partido respecto a la política de empleo

por eso efectivamente nosotros en lo que yo he venido a decir

que no coincidamos porque ya sabíamos que especialmente en una materia como esta

he utilizado o he expresado cuáles son mis ideas que usted no comparte como usted también utiliza algunas expresiones que se podrían

de su propia ideología y de su propio pensamiento a nosotros no nos parece correcta esa comparación que hace usted entre

en este tema porque nos da la sensación que parece que a ver dónde estamos

que estamos absolutamente jorobados en málaga

usted dice que el empleo público se paga con lo privado yo le digo que no solo

un sector público que no solo genere gastos no puede haberlo nosotros pensamos que sí y por lo tanto sea autosuficiente nosotros pensamos que sí porque yo he hablado sectores públicos que generen también otros servicios no solo los esenciales por lo tanto no estamos de acuerdo tampoco con esa afirmación y desde luego

la financiación de lo público a través del sector privado no entendemos sus políticas fiscales que normalmente vienen a facilitar

pues puedan pagar menos impuestos de los que deberían

la propuesta de reparto del empleo que efectivamente es muy vieja y

lo defendemos efectivamente desde hace muchísimos años no es ninguna ocurrencia

y yo lo dije también el primer día que intervine aquí en la investidura del lehendakari hay muchísimas y muchísimos trabajadores que nos vemos obligados

más de cincuenta horas a la semana entonces repartir esas horas de trabajo en más empleos no es ninguna ocurrencia es una propuesta es una propuesta concreta que se podría llevar a la práctica y yo creo que es una propuesta además

ocurrencia izquierdista para nada los agentes sociales bueno nosotros pues sí también somos partidarios de que participen los empresarios desde luego aunque yo

en que participen los sindicatos por una razón nosotros lo vemos desde una óptica desde la óptica de los trabajadores y entendemos que los sindicatos son los principales interesados porque están compuestos por los y las trabajadoras y son los principales interesados en que haya

y ahí es la parte que me parece importante del debate y es la parte que me gustaría que los grupos que apoyan al gobierno se diferenciasen de ustedes

las políticas de empleo a futuro no van a ser suficientes

reduzcan las tasas de desempleo y por eso hacía referencia al señor rosell no sé quién era su candidato dentro de la patronal o si lo tenía pero yo le considero mucho más cercano al señor

que a las mías y el modelo que se nos plantea para salir de la crisis no solo en euskadi y no solo en el estado español sino sobre todo

es ir a un nuevo mercado de trabajo donde las condiciones de las y los trabajadores sean

que anteriores a la crisis y se recuperarán

pero si seguimos por ese camino no se recuperarán las tasas de condiciones de trabajo que ya de por sí eran malas antes de la crisis

de este debate y en lo que me gustaría que los partidos que apoyan al gobierno y en especial al partido socialista y obrero pues me gustaría que les

sí que coincido con usted en una cosa que ha dicho si el gobierno sigue haciendo lo mismo iremos a peor

han llegado el grupo elkarrekin podemos y

que en tres meses se redacte un plan de empleo

me da la sensación que ustedes y nosotros no vivimos en la misma órbita

y es tremendamente complicado cumplir con todo lo que ustedes piden con un proceso de participación

un listado de participadores en ese proceso para hacerlo

de que es mucho más prudente no correr y hacer las cosas bien a la primera

a nada en cualquier caso hablan ustedes también de redistribución de racionalización de empresas de empleo público

es cómo porque yo me podría poner igual de utópico que usted que es estupendo

hacer un discurso maravilloso pero que después no sirva para nada y esa es la realidad en fin yo prefiero ser práctico prefiero ser pragmático

hacer un buen diagnóstico y poner en marcha medidas concretas sin entrar en utopías claro que lo ideal sería lo que nos propone usted pero es posible

que les hago y se ciñe prácticamente al empleo

es que este programa marco va mucho más allá de lo que supone el empleo es un programa mucho más transversal mucho más amplio mucho más ambicioso si me lo permite

todos vamos a poder hacer aportaciones bien de manera directa

este gobierno no tienen ninguna pega en reunirse con nadie o que incluso lo pueden hacer de manera indirecta en la medida en que todos y cada uno de los grupos políticos que componemos esta cámara

me consta por lo menos de mi grupo y del otro grupo que sustenta el gobierno

querer tutelar al gobierno una cosa es su labor de fiscalización de control al gobierno y otra cosa es su ambición por tutelar la labor del gobierno si ustedes quieren tutelar la labor del gobierno yo les invito a que entren en un proceso de diálogo de negociación

pero que no intenten tutelar desde la oposición hacen referencia como siempre

dentro del reglamento y que en fin le han debido coger ustedes gustillo al artículo ciento noventa y nueve

con el que el gobierno como no podía ser de otra manera va a cumplir

volviendo a la utopía fían casi todo al empleo público y de verdad les digo que creo que de alguna manera es hacerse trampas al solitario en la medida en que creo que ustedes también serán conscientes

no se soluciona el problema global que tenemos espero que lo comparta

a la representante del grupo eh bildu en fin bienvenidos al diagnóstico les digo bienvenidos al diagnóstico

tres años cuando la crisis estaba azotando con toda la crudeza del mundo y ustedes gobernaban en la diputación foral de gipuzkoa hubo dos grupos junteros como fueron el grupo juntero socialista y el grupo nacionalistas vascos que pusimos encima de la mesa

que en voz de la portavoz de su gobierno lamento que nuevamente le toque a usted

fue calificado como algo ni necesario ni urgente

y aquel plan salió adelante con los votos como decía del partido socialista y el partido nacionalista vasco entre otros grupos se lo pasamos al gobierno

no gastar ni un duro de los cincuenta millónes que estaban presupuestados y no hacer absolutamente nada por tanto bienvenidos al diagnóstico y bienvenidos a la tarea y a la labor

en solucionar los problemas que tenemos en este país ustedes decían que el plan será insuficiente que en fin han hecho ustedes una serie de calificaciones que me parecen si me

yo esperaría a tener ese plan encima de la mesa a calificarlo a analizarlo

a hacer las correspondientes aportaciones que por supuesto también las espero de su grupo para poder calificarlo como decía y definirlo como ustedes estimen

creo que esta tarea no es únicamente del gobierno no creo que sea únicamente de los grupos que vamos a sacar adelante esta propuesta sino que creo que es una labor de todos y espero que a lo largo de estos seis meses y sobre todo cuando tengamos este programa marco encima de la mesa todo seamos desde la objetividad desde la lealtad y desde el espíritu constructivo
de hacer aportaciones para poderlo sacar debidamente adelante gracias eskerrik asko

existiera una varita mágica pues evidentemente no existiría paro ni en euskadi ni en burgos ni en madrid

gobernada por diferentes partidos políticos está claro que el empleo no se genera por decreto ni por decreto ley

lo que nosotros entendemos es que son las instituciones las que tienen que poner los medios los mecanismos para crear las condiciones las garantías para que haya cierta estabilidad y se pueda generar empleo a nuestro juicio

el empleo se crea fundamentalmente por los y las empresarias

y para ello lo que deben hacer las instituciones es ayudar estar

para que se pueda ir generando más empleo respecto al tema del empleo público

bonito hablar de empleo público que hay que crear más empleo público desde las instituciones también el tema de la racionalización y redistribución

de los sueldos y salarios o eso que se queden como están creo que está muy bien especificar todo esto o por lo menos mencionarlo pero sin determinar cómo quieren llevarlo a cabo que mencionar e ir de utopía en utopía

muy difícil de llevarlo a la práctica porque allá donde están gobernando no creo que lo estén haciendo tampoco por lo tanto

de gobierno respecto al tema de los planes

a veces a algunos o algunas representantes se les olvida la responsabilidad y la iniciativa de realizar un plan de gobierno es del gobierno como tal y por supuesto y lo hemos dicho en la primera intervención y el gobierno lo está demostrando en el día a día

entidades agentes económicos y sociales que estén dispuestos a aportar a reunirse a aportar y a ser

ese plan de gobierno iniciativa del gobierno para poderlo mejorar y poderlo traer a este parlamento exponerlo y una vez visto

qué es lo que creen que debiera de ser mejorado etcétera pero el plan es una iniciativa del gobierno y el gobierno lo trae aquí

y se explica pero no olvidemos cuál es la labor de cada uno aquí

y la responsabilidad de presentar ese plan es del ejecutivo que por supuesto y lo ha dicho contará con todas las aportaciones de todos los

de instituciones porque por supuesto que creemos en la colaboración interinstitucional las diputaciones de eudel también señor damborenea y de todos aquellos agentes económicos y sociales que quieran participar sindicatos patronales etcétera pero también lo decía que para que dos puedan hablar y dialogar que pueda haber un diálogo por lo menos tiene que haber dos partes y ambas tienen que estar convencidas

a intentar llegar a acuerdos para entre todos y todas conseguir que ese plan de empleo sea lo más efectivo posible porque creo sinceramente que en eso
estamos todos y todas de acuerdo besterik ez eskerrik asko arregi

señor damborenea dice usted que el empleo lo crean los empresarios entiendo que también las empresarias

que se encargan de que ese empleo sea de calidad es donde surge en ese diálogo de entre las dos partes es donde surgen las garantías

por si surgieran dudas de que las cosas pudieran ir a peor sería interesante que pudiéramos establecer unas garantías de inicio sin más

han mencionado ya en varias ocasiones tanto por el señor damborenea como por la señora arregi a los sindicatos como únicos causantes

y es verdad que los diálogos tienen que estar presentes las partes pero para que eso se dé las posturas tienen que ser también de las dos partes no solamente de una de las partes

de gipuzkoa aunque las competencias en materia de empleo son bastante diferentes en el gobierno vasco y en la diputación foral y por aclarar

tenía usted un error porque se plantea una evaluación en tres meses y un plan en seis si el motivo

por cierto al que nadie me ha invitado ni a nuestro grupo era el tiempo podían haberlo comentado sin más y nos pregunta usted el cómo

la responsabilidad de hacer un plan es del gobierno de todas formas tampoco nos aclaran ustedes ese cómo porque aquí estábamos estableciendo otra cosa nosotros no queremos ni nosotras

en un reto que se ha definido como de país y por cierto esta misma fórmula esta misma fórmula que se proponía para este debate enunciando

la colaboración con otros agentes y todo este tema esa misma fórmula es la que hemos acordado

de lanbide son fórmulas muy similares con respecto al artículo ciento noventa y nueve pues la verdad es que sí me gusta porque es el que garantiza el cómo se va a formular y si nosotros lo tenemos que retirarlo tendrá que también retirar el señor erkoreka porque es de sus proposiciones de donde lo hemos copiado sí señor andueza

y a la señora arregi yo creo que yo ya le mostré mi voluntad

que las diferencias en este sentido son mínimas y es

un simple gesto de garantizar determinadas fórmulas lo que pasa que aquí se ha preferido el acuerdo fácil era mucho más cómodo el acuerdo con el pp porque el planteamiento que se hacía ahí

pero también desde mi postura entenderán ustedes que nosotros queremos ser más ambiciosas no hay

otro misterio en ese sentido es el acuerdo barato es el acuerdo más fácil y en esta ocasión como no había alternativa han recurrido a él pero esta misma fórmula es la que hemos acordado para el debate de la rgi